el uno de agosto del dos mil catorce el consejo de europa puso en marcha el protocolo de estambul y lo importante de este protocolo

por fin la violencia machista era reconocida como una violación de los derechos humanos y dejaba de convertirse en un asunto privado haciendo responsables a los estados de actuar en su contra y además les exigía no solamente que actuasen sino que si no lo hacían

el protocolo deja claro clarísimo que no se acepta ningún tipo de violencia contra las mujeres y que en consecuencia la legislación de cada estado

perseguir prevenir y adoptar medidas en todos los órdenes incluso con modificaciones legales para proteger a quienes sufren

eso sino básicamente señalaba que los que sufrían directamente esa violencia si eran niños o niñas o menores tenían que ser doblemente

del convenio que hemos hablado habla de las medidas de protección

el artículo treinta y uno habla de la custodia y de las visitas y señala expresamente que las partes tomarán las medidas legislativas y otras necesarias

de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos se tengan en cuenta todas las actuaciones que haya habido en relación con asuntos de violencia machista y el apartado segundo establece que dentro de esas medidas incluso se tendrán que tomar medidas de carácter legislativo

de visita ponga en peligro los derechos y la seguridad de los niños de las niñas y de las víctimas hori da lege

hemos visto cómo una mujer en bilbao ha sido supuestamente o presuntamente porque todavía no hay juicio

hemos visto cómo niños pequeños y pequeñas han sufrido

hemos visto que están cada poco tiempo saliendo a la palestra más abusos y más actuaciones en relación con esta cuestión

martxan jarri behar direla honekin amaitzeko queremos tener un instrumento legal que nos posibilite proteger a las víctimas de la violencia machista por eso proponemos el cambio

proponemos cambiar el artículo tres introduciendo un párrafo en el cual digamos algo parecido

en una causa de violencia de género en cualquiera de sus modalidades legales y se haya adoptado alguna medida de protección respecto a la víctima o cuando la causa que se lleve adelante lo sea por violencia contra el menor o la menor sobre quien deba de versar dicha medida

de los derechos y obligaciones de los progenitores en relación con los derechos de visita proponemos añadir un artículo nueve bis a esa ley

suprimir el apartado tercero del artículo primero del artículo once del texto inicial proponemos que en cualquiera de estos casos

alguno de los progenitores que tenga que ver con violencia machista no se dé no se pueda acordar el derecho de visitas

hobetzeko aukera izango dugula no digo que la propuesta que yo hago sea la mejor es la que se nos ha ocurrido

parlamentario que no tengo ninguna duda que vamos a llevar adelante porque espero que todos los grupos de la cámara apoyen esta proposición podamos mejorarla podamos cambiar las cosas que nos parezcan necesarias y podamos hacer que

esta propuesta que hacemos vamos a darle paso a la ley a mejorar la propuesta porque entiendo que el fin lo merece porque es nuestra responsabilidad

para explicar el sentido afirmativo de mi grupo a la toma en consideración de esta proposición de ley cuya

que la finalidad pretendida que como ha dicho la proponente es la lucha contra la violencia

que tengamos a nuestro alcance porque es verdad que nada parece ser suficiente pero que en españa hemos visto cómo se han

importantes como la ley orgánica uno barra dos mil cuatro de medidas de protección integral contra la violencia de género y en los trece años de vigencia de esta ley se han incorporado modificaciones importantes entre ellas cabe destacar la

de modificación del sistema de protección de infancia y la adolescencia relativa a

con hijos e hijas menores de edad y menores sujetos a tutela guarda o custodia de las víctimas de violencia de género

la protección de los menores de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género constituye uno de los ejes del pacto de estado aprobado por unanimidad en septiembre de dos mil diecisiete porque exige una respuesta más urgente según la macro encuesta de violencia contra la mujer realizada en dos mil quince del total de mujeres que sufren o han sufrido violencia física sexual o miedo en sus parejas y ex parejas

en el momento en el que se produjeron los episodios el sesenta y tres por ciento casi el sesenta y cuatro por ciento afirmó que los hijos e hijas presenciaron o escucharon algunas de las situaciones de violencia

eran menores de dieciocho años cuando sucedieron los hechos coincido con el criterio expresado por el gobierno

por la iniciativa que como decía no sería otro que la protección de hijos o menores que están a cargo de una víctima de violencia de género es plausible

voto favorable a la tramitación de esta proposición de ley cuestión distinta es el medio o la mayor o menor eficacia y eficiencia del medio elegido para alcanzar

con esta propuesta el objetivo es decir cuestión distinta a nuestro juicio es el contenido de la modificación propuesta porque tal y como señala el propio criterio del gobierno como consecuencia de la convalidación por unanimidad con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho el real decreto ley nueve barra dos mil dieciocho de tres de agosto se está tramitando en el congreso

que no solamente afectará a las cuestiones concretas hoy aquí planteadas el régimen de visitas y custodia compartida en los casos de violencia de género

a otras leyes conexas o que guardan relación con la materia así en el boletín oficial de las cortes generales de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho se han publicado el índice y las cien enmiendas del articulado en el que se han formulado

parlamentarios treinta y tres de ciudadanos veintinueve de podemos dieciocho del partido socialista catorce del partido popular y cinco del partido nacionalista vasco por el grupo mixto precisamente en el que está eh bildu solo se ha presentado una enmienda y que

según el parecer del gobierno también la modificación de la ley

de estado es mejor con respecto a las cuestiones

no ha sido objeto de enmienda alguna por parte de los grupos parlamentarios

más ambiciosa está dotada de un mayor rigor técnico y además puede no plantear problemas de constitucionalidad porque no olvidemos que existen ya por ejemplo por el juzgado de primera instancia e instrucción de eibar una cuestión de inconstitucionalidad planteada precisamente con relación a nuestra ley y bueno pues

el abrir el melón de modificar esta ley puede llevarnos a que en algunos supuestos si no hilamos fino

que estamos de acuerdo con el objetivo presentado que para lograrlo probablemente hay que hacer modificaciones en nuestra ley

cuestión distinta y lo sabe la proponente porque ya se lo hemos comentado es el contenido y que en su caso
perfilaremos a través de las enmiendas oportunas muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

egun on guztioi buenos días a todas y todos la ley

cuando fue aprobada el treinta de junio del dos mil quince tampoco obtuvo el aval de otros grupos políticos de la cámara

innecesaria e ineficaz calificativos que explicamos con claridad en aquella sesión parlamentaria en la que se debatió esta es una ley en la que se puso bajo un tamiz a nuestro juicio equivocado

se legisló la custodia compartida como un instrumento de igualdad

será la igualdad en el ejercicio de las corresponsabilidades compartidas de los progenitores desde el nacimiento de sus hijos las que determinarán en el momento en el que se rompe la relación de sus padres

que hay que proteger que es el del interés del menor cuál será el otorgamiento de la custodia más adecuada si será la compartida o no lo será y no al revés que fue un poco lo que paso con aquella ley los socialistas consideramos lo dijimos entonces lo décimos ahora y lo seguiremos diciendo que el prisma que debe de enfocar cualquier regulación que afecte a la situación de los hijos y las hijas durante y después de la relación de sus progenitores debe ser la de la protección y la garantía de sus intereses de los intereses de los menores a nuestro entender y al entender de otros grupos también en aquel debate parlamentario

individual y por tanto la mejor custodia se dará individualizando cada situación hoy eh bildu nos está proponiendo una modificación de aquella ley y creemos que otra vez se desenfoca el prisma desde el que hay que hacerlo

tal y como consagró la ley uno barra dos mil cuatro y así la menciona basa la propuesta en la ausencia de una perspectiva de género en la administración de la justicia por parte de los tribunales creemos que el prisma que tiene que enfocar esta modificación de la ley será siempre la protección del interés del menor y no

la redacción concreta que han realizado los proponentes de los artículos que pretenden enmendar pero sí compartimos y por eso nuestro voto favorable la necesidad de reflexionar y analizar la aplicación de esta ley

un camino que tal y como se dice en la proposición de ley ya se ha empezado a recorrer en estudios que se están realizando por operadores jurídicos y por operadores que no son jurídicos

y creemos oportuno que en este parlamento se abra un debate que ya está en este momento sustanciándose en el congreso y en el senado

socialista en el desarrollo que se está realizando del pacto de estado contra violencia de género también con un objetivo claro en ese

y para ello sabe usted perfectamente que se está tramitando la modificación de la ley de protección integral contra la violencia de género con un objetivo concreto que es regular

en regímenes de visitas como en régimen de custodia con los hijos e hijas en determinadas situaciones de violencia de género creemos que el análisis y el debate es necesario

con esta modificación de la ley también somos conscientes de los límites competenciales también se ha mencionado desde esta los límites competenciales que tiene este parlamento y creemos oportuno poder mejorar la protección que esta ley en este momento otorga a los menores

en lo que es el objetivo a perseguir que es proteger a los hijos y a las hijas eskerrik asko castelo

este parlamento pueda debatir y avanzar en otro pequeño cambio que es tan necesario para dar un paso más en la protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes que están viviendo situaciones de lo que la ley llama violencia de género hoy volvemos a hablar de violencia hacia la infancia y adolescencia y queremos aprovechar

en primer lugar para responder algunos mensajes alarmistas infundados y retorcidos que se aprovechan de la

promover el recorte de libertades y políticas de seguridad de corte regresivo y xenófobas señoras y señores teniendo en cuenta los datos

se publican año tras año el principal problema de seguridad

el coco no es un joven desconocido en situación de exclusión social señoras y señores el aumento constante indiscutible

por abusos sexuales y por violencias machistas demuestran que el principal problema de seguridad para más de la mitad de la población para las niñas

adultas está en sus casas en las escuelas o en las familias y el coco es el patriarcado y sobre todo

que las niñas niños y las mujeres son de su propiedad y están para satisfacerlos en todo el aumento del número de denuncias se lo debemos al trabajo y sensibilización del movimiento feminista y a una sociedad vasca que está avanzando

y miedos está poniendo nombre y palabras a las formas de violencias que hace tan solo unos años estaban cubiertas por un manto de silencio e impunidad

ante las últimas denuncias por abusos sexuales que se han hecho públicas algunos

salesianos de bilbao aquellos que fueron compañeros de colegio de los denunciantes están poniendo en práctica el lema de yo sí te creo quieren mostrar públicamente que los denunciantes no están solos compañeros ponen en práctica el yo sí te creo a través de una convocatoria de concentración

de deusto manifestamos desde aquí todo nuestro apoyo a los denunciantes y a sus allegados

de la misma forma que debemos escuchar a las víctimas de abusos sexuales también debemos escuchar a las niñas niños y adolescentes que viven situaciones de violencia machista en sus casas que son víctimas de esta violencia y deben ser atendidas y protegidas como tales

legales en este parlamento además sin ir más lejos tenemos unos cuantos acuerdos para mejorar la atención de niñas niños y adolescentes que son víctimas de violencia observamos

por ejemplo el pacto de estado contra la violencia de género aporta una batería de medidas interesantes para proteger a los menores de edad en este parlamento llegamos a un acuerdo

impulse la puesta en marcha de aquellas medidas del pacto que puedan mejorar los servicios y prestaciones que tenemos en euskadi todavía no hemos recibido ninguna novedad al respecto otro ejemplo en una comparecencia la consejera beltrán de heredia y también a través

que no tiene el registro de niñas y niños víctimas de violencia de género que pasan por comisaria en euskadi no se conoce cuantos

son ni quiénes son de esta forma las administraciones públicas vascas no están dando respuesta a sus necesidades

información sobre violencias machistas para que se registre y se dé respuesta a todas las víctimas teniendo en cuenta la actualización de la normativa de los últimos años

de este no tiene nombre la verdad y si no son considerados desde un principio como víctimas después en los procesos judiciales existe el riesgo de que se establezcan custodias compartidas y visitas con un señor que es una amenaza para la integridad emocional psicológica

la violencia machista hacia niños niñas y adolescentes violencia por cierto

nosotras votamos sí porque consideramos que es necesario debatir analizar y encontrar nuevas y mejores soluciones para proteger a las niñas
a los niños y a los adolescentes de la violencia machista en la familia eskerrik asko eskerrik asko arana

familia harremanei buruzko legea aldatzen gure ustez hori ez da bidea nos parece en este sentido que la iniciativa pretende matar moscas a cañonazos la exposición de motivos establece la ausencia de perspectiva de género en la administración de justicia con fatídicas consecuencias para los niños y niñas

la importancia de la formación en este sentido pero insisto ello se consigue mediante la modificación de la llamada de ley de la custodia compartida

se menciona que el código penal deja en manos del juez la valoración del peligro ante situaciones de violencia machista a la hora de fijar el régimen de visitas criticándose que no es determinante en muchos de los pronunciamientos judiciales y que debiera de serlo eta hau

iniciada por medio de una iniciativa legislativa popular tuvimos la oportunidad de escuchar muchas y diversas opiniones respecto a la conveniencia o no

la ley es ambiciosa busca el bienestar de la descendencia de parejas que se rompen procurando que puedan relacionarse en igualdad de condiciones con sus progenitores siempre

una serie de condicionantes que los y las juezas han de tener en cuenta a la hora de redactar sus fallos legegileok kontutan izan genuen genero indarkeria

zaintza partekatua ez ezartzea es evidente la voluntad del legislativo de no otorgar la custodia compartida en los casos en que exista violencia de género

propia ley la expresión indicios fundados por lo tanto está claro que la ley ya contiene mecanismos suficientes para no otorgar la custodia compartida como

única y exclusivamente en los apartados relacionados con esta grave problemática legeak baditu bere tresnak eta arauak epaileei

ipintzeagatik hoy en este pleno retomamos actividad parlamentaria y desde elkarrekin podemos lo hacemos con fuerzas e ilusión y lo hacemos contentas porque el segundo punto de hoy sea una iniciativa legislativa

con cada iniciativa popular se debería hacer un recibimiento en este parlamento con sumo cuidado con mimo incluso venga de donde venga siempre que respete los derechos humanos porque todas nosotras sabemos muy bien el trabajo y el esfuerzo que supone generar una iniciativa legislativa cuando además

de miles de personas para nosotras la iniciativa popular es el mejor instrumento de democracia semi directa que tenemos y por lo tanto ni más ni menos una joya un mecanismo que deberíamos promover y recibir con los brazos abiertos porque hacen que esta institución sea más transparente y más accesible a la gente pero sobre todo porque traen las propuestas

también porque hacen que las decisiones de construcción de un país de este país sean más participadas porque abren el debate a más agentes y no queda solo bajo la influencia de quienes se mueven alrededor de los círculos de poder las iniciativas populares como la que debatimos hoy contribuyen sin duda a mejorar la calidad de la democracia por eso sería preocupante que hoy el partido nacionalista vasco el partido socialista y el partido popular volvieran a dar un portazo a esa participación ciudadana

de la ciudadanía sería preocupante que cerrasen las puertas de este parlamento a sus preocupaciones y a sus soluciones sería preocupante que cerrasen las puertas de una institución democrática a la voz de la calle apenas cuatro meses antes de que esos mismos partidos salgan a estas mismas calles

el voto que les permita seguir en las instituciones porque si así fuera con esta serían ya dos portazos a la democracia en menos de seis meses

ustedes autoproclamado gobierno del diálogo podemos discutir sobre si la iniciativa es mejor o peor pero en este debate se toma en consideración la ilp no es al contenido a lo que está diciendo que no están diciendo que no a la participación de cincuenta y uno mil personas que quieren que hablemos de esto en esta casa

es política como políticas serían las vías para darle curso a esta iniciativa llevamos en este parlamento meses diría incluso años debatiendo acerca de las necesarias reformas

una ventana para debatir una oportunidad para acordar y pactar

esa ventana a quienes se acercan a esta parlamento para aportar soluciones de avance

posición de agentes y movimientos sociales que luchan contra la pobreza y la precariedad

cierto bloqueada bloqueada porque no le gusta a nadie solo les gusta a ustedes

una consultora privada neoliberal con experiencia sobrada en políticas que benefician solo a las élites

ha manifestado su discrepancia y rechazo a la propuesta de su proposición de ley y participan hoy de la carta social nosotras décimos que sí décimos que sí a debatir soluciones que propone la ciudadanía décimos que sí

a un debate necesario y que está bloqueado por su negativa sistemática decimos que sí a abrir este debate en el espacio que corresponde que es el parlamento de todas y de todos es de sobra conocido que en este grupo llevamos tiempo proclamando nuestro deseo de ensanchar el derecho básico de cualquier persona a disfrutar de una vida digna de fortalecer ese derecho y de terminar con los problemas que tiene la gente para ejercerlo hoy aquí en euskadi

no otros intereses ni políticos ni electorales la ilp que se presenta hoy es un ejemplo de cómo se podría enfocar esta reforma un ejemplo de cómo ensanchar y fortalecer ese derecho

que nos garantice una cobertura suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas cuando vengan mal dadas para poder salir adelante cuando pasemos por una mala racha una red que nos dé a todas

por parte de las instituciones que precisamos para que nadie se caiga en la pobreza ni en la exclusión por falta de ayuda esta propuesta busca además por primera vez en euskadi

de la pobreza esta iniciativa elimina los recortes infames del año dos mil doce

de personas nos piden hacerlo en el año que ha subido la recaudación en este país un año en el que las haciendas han recaudado más de quinientos millónes por encima de lo previsto es hora de utilizar una pequeña parte de ese dinero en terminar con el déficit social que arrastramos desde la crisis de dos mil ocho porque es una cuestión de justicia social

y legítimo el derecho de cualquier persona a disponer de una red que le sujete cuando vengan mal dadas la garantía de ingresos es algo de lo que todas debemos sentirnos orgullosas un tesoro a proteger un derecho con mayúsculas que nos sitúa como un país solidario decente y que cuida a toda su gente por igual porque la rgi son hoy más de cincuenta mil personas que necesitan el apoyo de los servicios públicos para salir adelante

generalmente de mujeres con niñas y niños a su cargo son más de catorce mil personas pensionistas más de cuatro mil viudas casi cuatro mil menores de veinticinco años y casi diez mil mayores de sesenta y cinco

más de mil cien en enkarterri más de ochocientos en aiaraldea y nada menos que ocho mil trescientos treinta y tres en ezkerraldea las comarcas castigadas también tienen su reflejo en la rgi

son un reflejo de la sociedad vasca a la que ustedes están dando la espalda son miles de caras de historias de personas que lo pasan mal

y como yo personas por las cuales no podemos permitirnos dar pasos atrás pasos atrás como los que se hicieron en dos mil doce pasos atrás como los que se hicieron en dos mil diecisiete con esta ilp cincuenta y uno mil personas nos piden recuperar la cordura y dejar de jugar con el futuro

nos piden recuperar lo que nos debe llevar a todas a hacer política que es cuidar de las personas

y con la que esta iniciativa es profundamente respetuosa nos piden respetar y seguir la estela de la lucha de miles de personas que se implicaron en la ilp que dio lugar a este derecho

y se comprometieron con este derecho con coherencia y generosidad

de avance nos piden que a cualquiera de nosotras a cualquiera de los más de dos millónes de personas que vivimos en euskadi y que podamos vernos cualquier día en la situación de tener que cobrar la rgi podamos hacerlo nos piden que mejoremos el derecho la dignidad y los recursos seamos equitativas seamos justas miremos a la capacidad que tenemos y no focalicemos la sostenibilidad solo en la protección social invirtamos y permitamos que esta ley pase

en elkarrekin podemos queremos más porque en euskadi se puede más si el reparto desde luego es más justo para todas y todos y no se concentra en las manos de los de siempre

que su modelo socioeconómico se base en reproducir desigualdades o no acabar con las injusticias

pero desde esa honestidad consideramos que hoy toca ser valientes y dar un paso adelante para fortalecer el derecho hoy tienen tenemos una oportunidad clara aprovechémosla para desbloquear este tema y hagámoslo desde la mano de la ciudadanía

que hay que tener ojo con asomarse por aquí con una ilp porque tiene su riesgo esperamos sinceramente que ese riesgo no sea tal

que las iniciativas legislativas populares sean procesos sencillos que sean accesibles y que hagan que participar

no la pena que nadie se vea penalizado en lo económico porque nosotras no damos pase político a esto que nadie vea rechazada su propuesta antes de debatir sobre ella porque no podemos y desde luego en elkarrekin podemos no queremos pretender gobernar

hartzen dugu desde ese compromiso queremos trabajar para hacer de euskadi un sitio más justo

porque sabe que la solidaridad y la ayuda de todas va a estar ahí besterik ez mila esker eskerrik asko guanche

podría decirse que estamos en unas circunstancias con elementos muy similares

lo que luego terminó siendo la renta de garantía de ingresos pero

y con una experiencia la de todos estos años que determinan y mucho el debate y la reflexión conjunta que son tan necesarios en este momento en este contexto es verdad que escuchamos voces hablando de no dar pasos atrás y pidiendo avanzar

y me enseñó la importancia de parar y reparar para conseguir los objetivos con los que iniciamos la marcha hay veces que los que aun teniendo una finalidad muy clara

nos encontramos con improvistos las inercias nos llevan pero no siempre donde queremos llegar tomamos decisiones que nos alejan del objetivo

que nos perdemos y que hay que desandar lo andado para recuperar el camino

y retomar el camino correcto y creo que es una reflexión muy oportuna si observamos el devenir de las prestaciones sociales y del sistema de protección sobre todo desde el dos mil ocho

por todos esos recortes y endurecimiento de las condiciones que se han dado en los últimos años y que las han dado quienes en este momento reconocen y subrayan las bondades del sistema de garantía de ingresos

porque el sistema de renta de garantía de ingresos lleva el camino de convertirse en un sistema sin garantía de ingresos de perder todas sus garantías

además que la ineficacia de la gestión del sistema se encuentra también en entredicho toca parar y reparar porque esos procedimientos de gestión no responder a la realidad de las personas que viven situaciones de pobreza real y toca parar y reparar sobre todo relaciones porque en los últimos años el sistema de renta de garantía de ingresos ha avanzado pero siempre dando la espalda a movimientos y organizaciones sociales y los consensos en torno a la renta de garantía de ingresos esos consensos que propiciaron el inicio del sistema

para poner en el disparadero a la renta de garantía de ingresos y poner bajo sospecha a las personas que lo perciben y desprestigiar y deslegitimar el sistema

y las personas que lo perciben que está muy lejos de ser real y que ahora toca

toca parar y reparar porque hay ocasiones en las que parece que se hayan olvidado los compromisos morales esos compromisos con respecto a un modelo de articulación social con el que se inició

ofrece esa oportunidad de parar y reparar que ofrece esa oportunidad de parar reparar incluso reorientar porque si algo ofrece es una dirección norabide bat

ilp honi dagokionean nos encontramos como decía en un escenario muy similar al de los inicios de nuestro sistema de protección con posturas es verdad encontradas y apasionadas y con posturas políticas que parecen irreconciliables

toca debate toca negociación toca acuerdo y toca lucha toca reflexión conjunta toca acumulación de fuerzas con agentes sociales

una respuesta compartida a las situaciones de pobreza y exclusión

digno decente y solidario baina hori desde luego ez da lortzen

y sobre todo sin ni siquiera escuchar lo que las personas tienen que decir está claro que el gobierno opta por otras fórmulas el gobierno y los grupos que sostienen al mismo no parecen escuchar no parecen estar en la misma sintonía es más actúan con cierto desprecio a iniciativas como la de la iniciativa legislativa popular pero la verdad es que el gobierno tampoco está para echar cohetes en esta materia no está para despreciar las oportunidades de acuerdo que brinda

como la ilp es verdad que el gobierno los grupos que lo sostienen trajeron una propuesta de reforma de ley de la renta de garantía de ingresos una propuesta sin garantía por lo menos sin las garantías que tendría si la habría traído el gobierno

cuál es la fórmula elegida para su tramitación parlamentaria una fórmula

esos informes que ofrecerían garantías a cualquier ley y que además maniata

una propuesta que desoye las propuestas de las entidades de los agentes sociales y que tampoco se aborda con los grupos y que condiciona y limita las posibilidades de debatir y discutir

pero no por mérito de este gobierno no por el trabajo que ha hecho este gobierno para mantenerla abierta

ante la importancia y el alcance de esta ley dejando de lado elementos partidistas y electoralistas

y el entendimiento porque entendíamos que teníamos un compromiso moral y que tenemos un compromiso moral con respecto a todas las personas que están viviendo situaciones y experiencias vitales

una actitud generosa y responsable que ustedes hoy no van a tener

y que están detrás de esta iniciativa legislativa popular

gure ustez beste proposamen bat mahai gainean ere aldi berean edukitzea el gobierno vasco adquiere el compromiso en su calendario legislativo

en el segundo cuatrimestre de dos mil dieciocho tenemos que decir que el gobierno

el partido nacionalista vasco y el partido socialista no ha cumplido este compromiso y transcurrido y finalizado el año dos mil dieciocho el gobierno como gobierno no ha traído una iniciativa de estas características un proyecto de ley para su debate y su tramitación en esta cámara el gobierno por lo tanto no ha asumido la

que apoyan al gobierno el partido nacionalista vasco y el partido socialista los que presentaron una modificación normativa en forma de proposición de ley de la ley para la garantía de ingreso y para la inclusión social para nosotros este es un tema capital también tenemos que recordar que la pasada legislatura

tenía que haberse abierto el debate la pasada legislatura y no fue posible abrir el debate porque

que abrir entendemos que ya hay una iniciativa encima de la mesa entendemos que hay una proposición de ley aunque sí tengo que decir que a nosotros

este gobierno esta legislatura sí ha sido calificado de importante de relevante y que además era un compromiso adquirido en el propio calendario legislativo entendemos

un proyecto de ley con todas las garantías acompañado de todos los informes preceptivos y sobre todo además teniendo en cuenta que la proposición presentada por los grupos que sustentan al gobierno y que además fue anunciada

el día que esta parlamentaria realizaba una interpelación sobre esta cuestión al gobierno tenemos

en el documento diagnóstico de la situación y propuestas de modificación que ya presento la consejera en comisión en el año dos mil diecisiete por lo tanto la pregunta creo que es muy obvia tras dos años de gobierno encima de la mesa desde el grupo popular no entendemos que este gobierno no sea diligente no haya asumido la responsabilidad de traer un proyecto de ley sobre tan relevante pero obviamente cuando se comience la tramitación de esta iniciativa si se toma en consideración

del grupo popular es articular todas aquellas medidas y poner encima de la mesa todas aquellas propuestas que entendemos tienen que tratar de configurar un sistema justo eficaz y sostenible y desde luego corregir las múltiples defunciones

perdón las disfunciones que en este momento presenta el sistema falta de controles en cuanto a la identidad de los perceptores acreditar el requisito de la residencia efectiva el destino de las prestaciones y que

al cumplimiento de los fines para las que han sido otorgadas temas de gestión problemas de gestión clamorosos y finalizo señora presidenta pero creemos que el sistema falla

el sistema al servicio de la empleabilidad un sistema que se basa en el doble derecho el derecho a recibir prestaciones económicas las previstas en la ley pero también el derecho a la activación laboral

a que lanbide diseñe itinerarios personalizados para que

alternativa y una salida para todas estas personas creemos que por lo tanto el diagnóstico está realizado y lo que falta es poner soluciones encima de la mesa el partido popular las tiene

meses obviamente las pondrá encima de la mesa para que todos

sepan cuáles son y podamos establecer un debate sincero un debate constructivo en torno a esta cuestión pero eso sí modificando sustancialmente la regulación actual que como digo
falla clamorosamente en muchos de sus aspectos eskerrik asko garrido anderea

sí gracias presidenta por nuestra parte

la presencia de las personas que han planteado ante esta cámara hoy esta iniciativa legislativa

en coherencia con las dos propuestas a las que afectaría y que llevan nuestra firma pues afectarían

que está en pleno desarrollo reglamentario y a la reforma de nuestro sistema de protección social que en estos momentos cuenta con una proposición de ley para la garantía de ingresos y para la inclusión presentada por los grupos

vascos y cuyo objetivo es mejorar la ley actual y corregir

disfunciones detectadas en los diez años de su aplicación y que está a la espera de que los grupos de la oposición que nos pidieron paralizarla en el pleno de junio del dos mil dieciocho

a darle cauce dentro de la misma se aborda una reformulación del sistema vasco de garantía de ingresos en su conjunto de la ley de garantía de ingresos actualmente vigente la ley dieciocho barra dos mil ocho de una forma coherente y global y en ambas han tenido

porque los socialistas creemos en la participación ciudadana a la hora de encauzar nuestras normas

reflexión podemos compartirlas podemos aproximarlas pero no tiramos a la basura ninguna de las aportaciones tampoco las que se han pretendido con esta iniciativa

son enmiendas que se pueden plantear o que incluso en su momento se plantearon y no fueron objeto de acuerdo pero no despreciamos esta participación quiero recordar en este sentido que la ley de vivienda que hoy se nos proponía reformar

y surgió a partir de un proceso participativo en euskadi liderado por el entonces y ahora consejero iñaki arriola bajo el título en vivienda todas las opiniones cuentan tan inédito

un premio por naciones unidas en el dos mil doce y tan innovador era que con las aportaciones de ochenta organizaciones sociales y entidades de todo tipo se acordó el pacto social de vivienda dos mil diez dos mil veinticinco es decir es un pacto que quienes lo suscribieron quisieron que perdurará en el tiempo un tiempo en el que aún estamos con una mirada

y con esa misma mirada y sobre las bases de ese pacto se elaboró la ley que debió de esperar una legislatura más para conseguir la aprobación de este parlamento no fue fácil

entre quienes compartíamos la ambición de desarrollar desde nuestras competencias

constitucional del derecho a la vivienda lo conseguimos por la mínima pero se hizo hoy esta ley

han puesto incluso después de su aprobación y hoy esa ley sigue sin tener parangón en ningún otro lugar de españa hoy nos toca

hacer desarrollar eso que tanto costó lograr y no cambiar aquello donde no hay consensos en cuanto a la renta de garantía de ingresos

tener este sistema de protección que tampoco tiene parangón en ningún otro lugar de españa gobierne quien gobierne e incluso donde gobiernan quien es hoy avalan

el impulso estuvo en el origen en la ley en vigor y en la participación que ha estado también en la elaboración y proposición de los grupos socialistas y nacionalistas mantenemos viva y que estudió una modificación del sistema de garantía de ingresos en su conjunto y de una forma global

pero en su origen hay un informe que ha contado con expertos ajenos a la política y que se han tenido en cuenta también en su elaboración pero además todo esos porque existe una propuesta desde abril del dos mil dieciocho porque todos los grupos de esta cámara sin excepción no solo la conocen sino que mantienen conversiones con quienes la hemos presentado esperemos que este debate se desbloque finalmente

y acordar demuestren su voluntad de querer acordarlas porque eso es lo que necesitan las personas a la que afectan

onartu genuelako además nuestra proposición de ley es mucho más ambiciosa que las modificaciones muy concretas previstas en la iniciativa legislativa popular aquella la proposición de ley revisa la ley en su totalidad dotando

a nuestro juicio la ilp se centra en tres o cuatro artículos muy concretos de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social edad tiempo de empadronamiento cuantía unidades de convivencia otros tres artículos de la ley de vivienda y a nuestro entender todo ello sin realizar un análisis profundo de la ley en su conjunto tampoco nos consta que hayan realizado un examen serio sobre la valoración económica de sus propuestas o por lo menos no se nos ha hecho llegar tal y como se le exige a la proposición de ley presentada por los grupos que sostenemos al gobierno tampoco entendemos la

ambas leyes de tan importante calado sin los informes

hemos tenido ocasión de escuchar en la comisión de empleo y políticas sociales la voz de muchas y distintas entidades a fin de que puedan expresar su opinión sobre la ley actual y aspectos a mejorar

de sus reivindicaciones habiendo sido algunas de ellas si no todas recogidas en la ilp el que no se haya tomado en consideración esta

podrán hacerlos suyos y presentarlos como enmiendas a la proposición de ley presentada en junio y pendiente de debate

respecto a la falta de democracia que se alega por no dar la posibilidad de debatir sobre el contenido de la iniciativa legislativa popular proposatzaileei

segurtasuna ez dagoelako bermatuta gure ontzian adiós y buena suerte pueden ahogarse ustedes pero es que

y ahora sin embargo ha plegado velas europaren aurrean

hay muchas maneras de matar pueden matarte meterte un cuchillo en el vientre quitarte el pan no curarte de una enfermedad

en una mala vivienda empujarte hasta el suicidio

llevarte a la guerra etcétera solo pocas de estas cosas están prohibidas por el estado

pero podemos añadir que también se puede matar dejando a su suerte

en el mediterráneo y eso como hemos podido comprobar tampoco está prohibido ni en el estado español

europeos porque también hay muchas maneras de hacer

señoras y señores parlamentarios buenos días mi grupo votará a favor del punto número uno

proposición no de ley y lo haremos por cuestiones de entendemos nosotros legalidad de normativa europea nacional internacional situación legal seguridad de los países

con puertos cercanos también que se niegan a recibir y dar refugio

factores que inciden de una manera esencial en algunas decisiones y que desde luego

discutir una situación que entronca con la situación de hecho y con la situación de derecho nosotros no vamos a rechazar a través de una proposición no de ley sin un análisis jurídico riguroso ni un planteamiento integral de la situación las decisiones que el gobierno de españa adopta en cumplimiento

y quizá también de compromisos adquiridos en el seno de la unión europea y de las razones de seguridad aducida que la señora portavoz de eh bildu minimiza y minusvalora pero que ahí están y forman parte de decisiones que adopta el ejecutivo y que podrán ser

tienen que ser aceptadas en un primer momento recursos parece que se han anunciado veremos la razón jurídica o no pero en cualquier caso no podemos nosotros oponernos a esa circunstancia y a esa situación

un gobierno en función de la legalidad que entiende aplicable estamos ante otra iniciativa

en el congreso de los diputados en el parlamento español o incluso en ámbitos como el parlamento europeo donde todos ustedes

de hablar de estas cuestiones que afectan a las normativas comunitarias o a las normativas

o cambiar legislaciones normativas exigir a países miembros de la unión determinados comportamientos debatir sobre los acuerdos europeos la legalidad de los mismos

en los países donde operan las mafias de una manera neutralizadora de las mismas

pero no puede ubicarse una iniciativa como esta en una cámara con el único fin de pedir al gobierno de españa además que actúe de una manera

de la legalidad si así lo ha valorado en el momento de adoptar determinadas decisiones entendemos que las decisiones

fundamentadas en compromisos legales en

y en ese sentido ahí habrá que analizarlas en este sentido y en dos medios de comunicación el pasado martes un jurista experto

decir en un análisis de la situación las mafias organizadas que controlan el tráfico de inmigrantes y refugiados se dedican a embarcarlos en artefactos carentes de las mínimas condiciones de

por mor del deber de humanidad y otro de legalidad marítima efectivamente una muy complicada situación con efectos con efectos claros y decía también el articulista el experto que nos encontramos ante un fraude de ley

los extremos del mismo y la tensión que se produce entre la actuación humanitaria y la situación que no es jurídicamente normal y correcta sino plenamente ilícita

deben de adoptar medidas para afrontar jurídicamente esta situación irregular bueno suponemos que eso estará en lo que son

y por eso nuestro planteamiento en esa cuestión

si nos permiten votación separada de los puntos nosotros anunciamos que votaremos a favor del punto número uno de la proposición no de ley

valoramos positivamente la intención de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la ayuda a los refugiados y migrantes y desde luego les instamos a que

en el sentido de acomodo a la legalidad en los permisos que deban recabar o

y que le afecta a todo el mundo por eso mismo ese margen de debate jurídico de debate normativo o de análisis normativo en relación con las decisiones que toman los gobiernos pero desde luego no podemos apoyar el resto de la iniciativa ya que si el gobierno de españa no encuentra acomodo jurídico a la actividad de los barcos descritos

vuelvo a decir podrá ser en los tribunales donde ya se han anunciado algunos recursos pero desde luego no en una proposición no de ley insisto hay otros foros para cambiar normativas o revocar compromisos internaciones y europeos habrá que acudir

lo hagan está claro que entre las contradicciones las

con sus acciones con sus declaraciones la confusión es lo que impera y por ello lo que hubiera sido más correcto probablemente desde un punto de vista político en la parte

los instrumentos de ayuda a las personas que emprenden esa entrada en europa por mar en el acomodo a la normativa y en el cumplimiento de los acuerdos europeos internacionales hubiese tenido más sentido explicar que clarificase de una vez en los bandazos sino que dé una explicación cierta sobre sus compromisos y sobre cómo va a atenderlos por otro lado como

objeto de ver lo que pasa están sobre la mesa recursos

recursos que ya han sido presentados por lo que hemos visto a través de los medios de comunicación por los propietarios de los barcos que los proponentes

han presentado recursos ante los tribunales y será bueno también desde un punto de vista también legal o normativo jurídico conocer también la posición de los tribunales de justicia en esta situación en el análisis de toda esta normativa que concurre aludida por razones de seguridad y por otras

en ese sentido quien tiene la razón definitivamente por eso mismo

la prioridad en este debate que nos lleva a esta situación pues tan grave y tan la prioridad sigue siendo desde un punto de vista europeo desde un punto de vista de política de la unión europea y de política en este caso también internacional

actúan esas mafias para neutralizarlas para controlarlas esa es

si hay algo de lo que tienen constancia plena los ciudadanos españoles también los vascos es del compromiso humanitario inequívoco del gobierno que preside pedro sánchez lo saben bien porque su primera actuación lo recordaba la señora agirre

abandonadas a su suerte en el mar por mucho que con este debate

y eso que es incuestionable el compromiso humanitario no es incompatible con el rigor a la hora de autorizar barcos y organizaciones que con su mejor voluntad quieran dar ese amparo y no es incompatible por mucho que en este pleno se intenten mezclar las cosas y por mucho juicio de valor que se incorpore a la iniciativa que queda bien a las claras en su justificación

además de que nuestras instituciones el propio gobierno del que formamos parte apoyen esta causa

o el español como es el caso que prevarique y lo que es incluso peor que prevaricar saltarse la normativa marítima vigente porque existe esa normativa

una normativa que saltándosela ponga en peligro con su autorización expresa a esas tripulaciones y a quienes pudieran rescatar

para hablar de la soberanía de euskadi y cataluña la ha mencionado también en su intervención

si un gobierno de una euskadi independiente daría permisos así saltándose a la torera los convenios internacionales en salvamento marítimo seguridad humana en el mar

no sé si ustedes lo harían pero desde luego no cuenten con los socialistas ni para ese gobierno independiente que anhelan ni para saltarse las normas ni para eludir los acuerdos internacionales que no es que nos afecten es que nos protegen porque son esos convenios los que ha estado analizando la dirección de la marina mercante que no es un organismo creado para reprimir

es que los vascos que sabemos mucho del mar estamos protegidos por esos acuerdos internacionales que dicen lo que dicen y como ya está más que argumentado la organización marítima internacional

en materia de búsqueda y salvamento marítimo y actuar en las no asignadas que es lo que tendría que hacer en este caso el aita mari exige un permiso de los países ribereños que no tiene y al no tener ese permiso tendría que cruzar el mediterráneo durante varios días para después volver hacía aquí hasta aguas españolas para desembarcar a los náufragos

comprometiendo la seguridad de la tripulación y los náufragos auxiliados estas y no otras son las razones

de todas las personas a las que pudieran rescatar no es seguro que lo puedan hacer y es seguro que no lo van a poder hacer en puertos intermedios porque ya sabemos la posición del resto

central de los salvinis y compañía esto no es desentenderse

esto y seguir trabajando con el resto de europa para que todos los países cumplan con las obligaciones humanitarias de rescate en alta mar cosa que no está sucediendo por desgracia

de que ofrezca puertos seguros y les admito que digan que pedro sánchez tampoco lo ha conseguido es verdad

que seguro que son mucho más convincentes pero no vale solo con el voluntarismo ni las buenas intenciones porque si fuera por eso que a nadie le quepa duda que seriamos los primeros en suscribir íntegramente esta iniciativa

como queremos que nuestros voluntarios lo hagan con todas las garantías las dos cosas y aquí en este parlamento no podemos actuar si no existiera el derecho marítimo internacional

y lo digo porque viendo esta proposición no dejaba de acordarme yo de que hace dos legislaturas también con un gobierno socialista en españa y algunos en esta cámara y en otras instancias

en donde nuestros barcos estaban sufriendo un acoso permanente y me viene a la cabeza como algunos decían que aquel gobierno socialista era insensible ante los secuestrados ante el sentir de todo un pueblo y que lo mejor era que interviniera el ejército el ejército español sí proponían que los atuneros se militarizaran

eran civiles sí un despropósito pues nos quedamos solos

actuación alternativa segura y eficaz proteger los barcos con seguridad privada y actuar en los puertos de origen de los piratas para evitar los ataques y nos acordamos de carme chacón y nos acordamos de cómo emprendió una acción protegida por las instituciones europeas

y nos acordamos de que el resultado fue mucho mejor de lo que algunos entusiásticamente defendían en este parlamento saltándose la normativa internacional

de seguridad en el mar y esto es lo que vamos a defender hoy también vamos a apoyar parcialmente su iniciativa el punto uno y el tres y nos vamos a abstener
en el punto dos eskerrik asko

incluida tu alma y la aplastan éramos ciento treinta y cinco en el barco

pero no teníamos suficiente pasamos casi veinticuatro horas en el mar antes del rescate nuestro barco estaba lleno de agua hasta la mitad todos estábamos muy asustados cuando caímos al agua hacia frio y estaba oscuro la gente tiraba de mí de mi ropa ali

ha sido difícil pasar por libia he visto tráfico de seres humanos violencia trata de mujeres

que hay mucho trabajo pero todo es mentira la mayoría son mujeres jóvenes dieciocho diecinueve diecisiete años les obligan a prostituirse oumar gambia

muchas de nuestras mujeres están trabajando en casas de libios como limpiadoras

no es lugar para quedarse hay rebeldes secuestran a la gente para que les pagues

y mientras te tienen con ellos violan a los hombres a las mujeres molestan a los niños

te matan no voy a olvidar esto lo que ha pasado no voy a olvidarlo en mi vida christiana veinticuatro años nigeria rescatada por el dignity estas palabras no son de ninguna

en muchos países del mediterráneo son palabras de personas rescatadas por barcos de los que todas hemos oído hablar el open arms el dignity el aquarius

se escucha aunque de ella se hable a diario hoy he querido que sean sus historias las de quienes sufren la indiferencia de los gobiernos europeos las que ocupen el lugar central de mi discurso

he querido que el mismo día que este parlamento toma una decisión que puede afectar a sus vidas y que de hecho afecta

bezalako pertsonen mina eta sufrimenduari amaiera eman ezinik hoy con este debate ponemos un granito de arena sin duda para que los barcos de salvamento humanitario salgan a defender en el mediterráneo el derecho a la vida de miles de personas

de los barcos de rescate como nos recordaban los integrantes de la plataforma ongi etorri errefuxiatuak junto con las personas pensionistas de bilbao este lunes con una versión de la canción de santa águeda

más de trescientos personas fallecidas trescientos treinta y nueve proyectos de vida ahogados en las puertas de nuestra casa más de trescientos personas que tal vez podrían haber sido salvadas aita mari lleva parado desde el dieciocho de enero y parece que va para largo saquen cuentas de cuántas vidas

eso sí murieron sin observadores ni testigos sin ojos que denuncien que ayuden a parar este genocidio en forma de vidas ahogadas un genocidio que se está dando en la puerta de nuestra casa y al que ni con esas parece que queramos mirar dos mil doscientos setenta y cinco personas con sus vidas sus historias sus anhelos y sus sueños desaparecieron

una de cada cincuenta y uno personas que se echaron al mar fracasaron por cada catorce que llega a tierra una muere que sepamos podemos callar ante esto podemos quedarnos de brazos cruzados o limpiar nuestra conciencia

pues sinceramente creo que no nosotras tenemos claro que podemos hacer mucho más y esperamos que euskadi españa y europa hagan más podemos poner fin a estas tragedias teniendo el coraje y la ambición de mirar más allá del próximo barco y adoptar un enfoque a largo plazo basado en la cooperación regional y centrado en la vida

porque salvar vidas en el mar no es una opción ni una cuestión política es una obligación ancestral no son mis palabras no son las del máximo responsable del acnur el alto comisionado de naciones unidas para las personas refugiadas

sería el colmo de la hipocresía de la europa cuna de los derechos humanos

pastor la unión progresista de fiscales que digo yo que algo saben de leyes ha mostrado su preocupación y ha sentenciado desde una perspectiva legal

es un acto político no administrativo que esta decisión política blanquea y convalida las políticas atentatorias contra los derechos humanos dicen y estoy citando textual que el despacho de un buque debe ser un acto administrativo no político

los cumplen el aita mari lo cumple por tanto

que la denegación del permiso de continuar constituye de facto una medida cautelar preventiva que impide al buque navegar hasta aguas próximas a libia principal puerta de entrada a inmigrantes supeditando la autorización de la salida del barco a la existencia de un acuerdo para el desembarco de los rescatados por las autoridades responsables de la zona

por muchos organismos internacionales de derechos humanos en esta situación se está obligando

imposible y eso es un criterio político porque son principios del derecho romano que la ley no te puede obligar a cumplir algo que es imposible

el señor ábalos ministro de fomento en diciembre felicitaba a salvamento marítimo por su veinticinco aniversario y mostraba un firme compromiso del gobierno

respecto al rescate de personas en diciembre sin embargo al mismo tiempo que definía este servicio como una red de protección para todas

tiñendo sobre las organizaciones de salvamento humanitario la pátina de sospecha de fraude de criminalización esperamos que lo del treinta y uno de enero

eso de que fuera de las costas españolas los rescates y las personas no son nuestra responsabilidad sinceramente espero y confío que el patinazo sea solamente del ministro y que lo que haya aquí hoy

aunque escuchando hoy al señor pastor parece que mi esperanza es de balde

presentábamos como enmienda enmienda que como saben hemos retirado en aras al consenso porque en estos temas es indispensable partir de los consensos no les voy a negar

las cosas también aquí porque me temo que este acuerdo pueda ser un pequeño brindis al sol que se quede en nada no obstante

que este acuerdo sirva que se dé pronto una reacción a la altura de miras de la ciudadanía que nos está reclamando solidaridad y compromiso a la altura de los compromisos que se dice que se tiene a la altura ni más ni menos que de los derechos humanos espero dugu

votar afirmativamente los tres puntos de la propuesta de la oportuna propuesta de euskal herria bildu

dramática que es del responsable médico del aita mari que hace unos días decía algo así como cuanto menos testigos haya en el mediterráneo más fácil será que hagan una política

pero que no tenga mucha vigencia en el tiempo porque también confiamos evidentemente que más pronto que tarde haya permiso para que tanto el open arms como el aita mari salgan y zarpen de barcelona y de bilbao respectivamente yo entiendo

para dar permiso a estos dos barcos de ong el primero era el permiso técnico de la marina mercante

acogerles cuando hubieran rescatado a los migrantes en el mediterráneo yo creo que estamos confundiendo el enfoque la cuestión

y es una cuestión más bien de derechos humanos hace una semana el diputado nacionalista

de fomento que el respeto a los derechos humanos debe ser el principio inspirador de cualquier acción de gobierno yo entiendo que haya rigidez por parte de la marina mercante en otros casos pero también entiendo que deba haber

no hablamos de un barco normal que por motivo de ocio o de negocio tiene una carga o tienen un número de pasajeros concreto y tiene un puerto del que zarpa y tiene un puerto al que llega

es que van a salir y que van a salir el open arms desde barcelona el aita mari desde bilbao y no saben nada más saben su rumbo aproximado el mediterráneo central pero luego no saben si van a volver a algún puerto

de acogida y tampoco saben si van a volver con cincuenta migrantes con cien o con doscientos

del aita mari es de ciento veinte personas pero yo no tengo ninguna duda de que si el aita mari se encuentra con una patera de doscientos cincuenta personas en medio del mediterráneo central no va aplicar la normativa de la marina mercante y va a decir ciento veinte y los demás os quedáis ahí va a coger evidentemente a los doscientos cincuenta entonces estamos hablando

y su finalidad es cumplir los derechos humanos y en segundo lugar porque son barcos que insisto no pueden declarar antes de salir su función su salida su destino su fecha de llegada

dependen de cómo estén las pateras y no saben nunca ni con cuánta gente van a volver a bordo ni a dónde van a volver

era el tema de los puertos evidentemente todos sabemos porque también se ha dicho aquí que no van a abrir sus puertos que libia tampoco es un puerto recomendable que el mediterráneo francés queda bastante al norte y bastante lejano y que solo quedan por lógica geográfica

de eso de que estos barcos van a volver a estos puertos pero si el ministerio de madrid está diciendo que no salgan los barcos quizás sea porque no quieren que vuelvan a sus puertos con lo cual estaríamos equiparando la acción del gobierno de madrid con la acción de los gobiernos de italia o de todos deseamos y todos queremos porque sería lo lógico que hubiera una legislación europea que habría un reparto europeos en proporción a cualquier tipo de unidad de población económica para que todos supiéramos cuántos países europeos se hacen cargo de cuántos migrantes pero tristemente no lo hay entonces hay dos soluciones o mantener amarrados a los barcos

o dejarles que partan sabiendo que puede que evidentemente acaben en cualquier puerto del levante español yo quiero repetir la frase

que el respeto a los derechos humanos es el principio inspirador de la acción de gobierno no estamos ante un problema técnico de navegabilidad de embarcaciones

ante un problema específico de la marina mercante

algún tipo de normativa pero yo creo que este caso la normativa tiene que ser un poco más

sobre todo por un aspecto importante y es porque la función de estos barcos no va a ser ni el ocio ni el negocio sino que simplemente va a ser rescatar vidas humanas y es mucho mejor que los rescaten

que no les rescaten es mucho mejor que en un barco en el que la navegabilidad se asegura con cien personas haya trescientos aunque estén hacinados que no que estén en las aguas

introducir el elemento de derechos humanos en lugar de introducir tantos aspectos técnicos

señor barrio señor pastor como dice el dicho quien hizo la ley hizo la trampa dos creo que han venido a hacer un poquito trampa a cuenta de la ley

qué ley o qué normativa ampara que los

apagados es por motivo legal o quizás es para no ver

no sé me gustaría saber señor pastor usted habla de prevaricar no sé el gobierno que usted sustenta ha financiado el aita mari no sé

cuáles creían que iban a ser las intenciones del aita mari sino las de rescatar gente entonces tampoco se entiende bien sabiendo que luego iba a cumplir la ley al rescatar personas entonces

eta orain ba sánchezen beldurrak izua eragin du porque si vamos a la ley creo que

a navegar y si se encuentran con una patera

parece que va a llover ese niño es suyo qué potxolo qué ojos más grandes tiene pero ya lo siento no lo puedo llevar

no es para rescate no estaría incumpliendo también la ley la ley marítima que obliga a rescatar los náufragos entonces pues no sé ya me explicarán cómo se soluciona esto por la ley yo creo que no hay ley que esté por encima de las personas eta

sí gracias señora presidenta bueno del debate de hoy hay varias cuestiones efectivamente

rescate de las personas que son echadas a las aguas del mediterráneo por las mafias en

que nos ocupa pero también hay un debate jurídico y hay un debate

y lógicamente no nos podemos sustraer al mismo y de las decisiones que toman los ministerios o los gobiernos de los países miembros de la unión europea en relación con algunas cuestiones que

pero que en definitiva están sustentadas en determinadas decisiones de acomodo a la legalidad es

la normativa tiene que ser más laxa o más relajada no sé yo creo que eso es incompatible un tanto con la aplicación pura de la

aplicar la ley y desde luego desde mi grupo entendemos que se den los permisos si se cumplen con las leyes y con las condiciones legales

si no se cumplen con las condiciones legales y en ese sentido eso es lo que nos lleva a tener esta posición de rechazo de lo que el señor

al gobierno de españa a prevaricar el gobierno de españa está entendiendo que está aplicando una normativa que afecta a estas embarcaciones y en ese sentido

qué decisiones sigue tomando el gobierno qué acomodo se dan a la legalidad marítima y vamos a ver qué decisiones también pueden tomar los tribunales en el los recursos que están presentados esa es una cuestión fundamental y vuelvo a incidir

y los países miembros en relación con la crisis de los refugiados de las personas migrantes en el mar tiene asignaturas pendientes lógicamente que sí es decir esperemos que haya acuerdos y que se

los compromisos que los estados miembros tienen en relación con las cuestiones pertinentes humanitarias

entendemos que es una labor fundamental neutralizar ese papel de las mafias allá donde

el tono del debate porque en tiempos de exabruptos y sobreactuación como vivimos

es de agradecer lo que sí me interesa volver a recalcar es el compromiso con este problema por parte del gobierno de españa porque no ha sido solo el aquarius el que llegó a las costas españolas porque no le dejaban recalar en otros puertos ha habido más barcos desde entonces

perfectamente que por cierto ha estado saturado de trabajo durante todo lo que lleva de año en el sur de españa y en el levante

porque se han reforzado y mejorado los servicios de atención a los mismos porque se han hecho anuncios que a mí me parecen importantes como la retirada parcial de las concertinas de las vallas de ceuta y melilla y todo eso implica compromisos en una lucha humanitaria es verdad que podíamos habernos quedado muy satisfechos y haber dicho venga vale

nos sacamos la foto y décimos que dejen zarpar al open arms

donde como todo el mundo sabe no tenemos esa opción

en su propuesta con lo que nosotros como repetía estamos parcialmente de acuerdo

a que dentro de la unión europea presione para la modificación de esos criterios inhumanos que plantea malta que plantea italia y que plantea también francia aunque de forma

el único que tiene todos los puertos abiertos es españa el resto no el resto los mantiene cerrados

desde el punto de vista humanitario y de distinta mirada a la hora de plantearse este problema por lo tanto nosotros repito nos solidarizamos con las ong y con los tripulantes de las dos embarcaciones que ahora mismo están retenidas en puerto que viene a ser el punto primero

para ayudarle a una resolución que es europea en gran parte no española ni italiana es europea es convencer a determinados

ni un solo inmigrante porque les acusan de todos los males del universo

es criticar a un gobierno que creo que está dando muestras de una sensibilidad que no han tenido durante muchos años los gobiernos en españa

pero sí que quiero decir algunas cosas la primera es que la tripulación del aita mari nos ha mostrado todos los permisos y tiene permisos por encima de lo que se le demanda en función del tipo de barco que es lo hicieron así de hecho pensando en que posiblemente hubiera exigencias por encima de lo que les toca ergo los permisos no son un problema son una cuestión de voluntad política

señor barrio es que esa justificación que usted hace de las mafias cuando habla de que les echan al mar hace parecer que los seres humanos son objetos y eso es muy malo es muy malo pero no solo es muy malo sea así o sea asao nada absolutamente nada de nada puede justificar que dejemos a la gente ahogarse en el mar

señor barrio no hay blancos ni negros ni extranjeros ni nacionales en el mar hay personas que naufragan el derecho internacional exige que les salvemos señor pastor por favor no saque pecho de la retirada parcial

mejor eso déjelo para otro día porque las concertinas parcial o totalmente las que pusieron ustedes las que ampliaron ellos y las que continúan y hoy están desmantelando a trozos

su misión eso está claro nació como un agente de los derechos humanos como un defensor y un mediador internacional en los conflictos y se ha olvidado

yo creo que si todos los países que conforman la unión europea son cobardes y asumen que no se puede hacer más o que no se puede hacer mejor

y yo creo que toca ser valiente y demostrar con hechos que podemos hacer más

toca ser ejemplo la tripulación del aita mari seguro que nos agradece el acuerdo de hoy yo reitero la necesidad de los consensos en este tema la necesidad de acabar con discursos histriónicos pero sobre todo creo que lo que toca poner en el centro es la defensa al derecho a la vida y si eso pasa por desgarrarnos la piel peleando

cobardes en casa merecerá la pena besterik ez mila esker eskerrik asko

zein alokairuarentzako dos mil diecisiete un treinta y dos por ciento más de lanzamientos de vivienda

de solo una subida del cuatro coma tres por ciento euskadi treinta y dos por ciento de subida el resto del estado español el cuatro coma tres

de las abusivas subidas del precio del alquiler lo vuelvo a decir

en el alquiler esos novecientos euros de media en bilbao esos más de mil en donostia ayer en el informe decía que había subido todavía más un seis por ciento

motela izaten ari da motelegia y de mientras el gobierno español ha fracasado también con la ley de arrendamientos

en este caso con nuestro grupo parlamentario de unidos podemos tan vitales como empezar a poner coto y limitar por ley del alquiler el psoe lo tenía fácil si quería que ese decreto se hubiera aprobado que era cumplir el acuerdo que tenía con nuestro grupo parlamentario pero una vez más entre mejorar la vida de la gente y cumplir con la sacrosanta ley del mercado

un mercado que es una selva de precios abusivos de prácticas abusivas por mucho que se rían ustedes porque ante esto la respuesta del gobierno vasco es lenta y la respuesta del gobierno de españa ha sido de nuevo ante esta subida de precios ante esta selva que es el mercado del alquiler y el mercado de la volver a elegir la ley del mercado y esta iniciativa que era muy concreta que no va a salir adelante hoy por lo menos por lo que ayer nos dijeron

que lo único que busca es unificar los distintos servicios que tiene el gobierno en materia de asesoramiento en vivienda tenemos a gente que tiene que peregrinar tenemos a gente que tiene que ir a bizilagun tenemos a gente que luego tiene que ir justicia al servicio de mediación

lo único que estamos diciendo con esta iniciativa es mejorar la coordinación del gobierno y

la propia acción de gobierno y mejorar la calidad de la atención

birkokatzeko y aquí lo vuelvo a decir era una iniciativa

hay que unificar la orientación y la atención en materia de vivienda tanto para las personas en situación de emergencia como para las que no

etcétera etcétera proponemos que sea el departamento de vivienda

en su funcionamiento este servicio unificado de orientación en materia de vivienda y además

el departamento de vivienda el que lo lidere que coordine con colegios y profesionales especializados en distintas materias relacionadas con la vivienda que ese asesoramiento se haga de una forma integral con arquitectos con abogados con administradores y administradoras de fincas etcétera

sociales y también evidentemente coordinar esto con los ayuntamientos y con la administración de justicia una atención lo vuelvo a decir unificada en materia de vivienda coordinada acabando con la actual dispersión y el mareo que para personas en situación de vulnerabilidad

en este mar de burocracia en este mar de trabas y en este mar de desplazamientos innecesarios y estos desplazamientos convierten algo que tendría que ser automático algo que tendría que ser una respuesta inmediata por parte del gobierno en un verdadero quebradero de cabeza en una situación además

pentsatzen jarraitzen dugu yo me preguntaría en este momento

debate qué voluntad tiene en este caso un departamento liderado por el partido socialista de euskadi en este gobierno de coalición con el partido nacionalista vasco qué voluntad tiene de hacer algo en esta materia

en anteriores sesiones y cuatro cosas genéricas más que muchas están también aprobadas en el monográfico de vivienda y cuando plantea además en uno de sus puntos renovar la ley de arrendamientos urbanos cuando sabemos lo que acaban de hacer en el congreso

sánchez por incumplir los acuerdos que tenía con la izquierda que muchas veces se le olvida qué voluntad tiene el partido socialista de euskadi cuando no es capaz de coordinar tres áreas que curiosamente y además no lo he hecho aposta tres áreas que proponemos que coordine este servicio unificado de orientación en materia de vivienda esta oficina de atención unificada en vivienda tres departamentos que gestionan ustedes justicia y kontsumobide con el consejero retortillo en posición de salida ni siquiera estos tres que dependen de sus tres departamentos

que vuelvo a decir que sería fácil de montar sería barata de montar y que seguramente arreglaría mucho de la descoordinación que hay en el gobierno y arreglaría además mucho de nuestros y nuestras ciudadanas que tienen este derecho a la vivienda si no cercenado sí muy muy muy muy muy limitado

y llevamos se va a acabar la legislatura y va todo súper despacio que si el decreto que si

a ver el informe ha pasado enero estamos ya en febrero varias cosas de las que tenía en plazo yo le pregunté en diciembre

entonces vuelvo a decir qué voluntad hay de poner todos estos recursos

compañeros suyos en aragón o en castilla la mancha los han puesto

para no poner en marcha acciones concretas como estas que estamos diciendo eskerrik asko

ari dira decía el señor martínez que

motelas pues yo creo que los que andan motelas son ustedes porque aquí muchas de las cuestiones que han comentado llevan ya

muchos años en marcha y lo que me sorprende es que ustedes que son tan enemigos de crear chiringuitos vengan aquí a proponernos a crear otro que según usted es

ya me dirá usted cómo en cualquier caso yo mire le agradezco que nos traiga aquí dos buenos ejemplos de buena gestión como son los ejemplos de aragón y de castilla la macha por cierto gobernados por dos socialistas

recordarle que la situación en euskadi es muy diferente entre otras cosas porque en castilla la mancha y en aragón no existía ningún tipo de servicios que atendiera estas necesidades y en euskadi ya llevábamos años trabajando por refrescarle un poquito la memoria

hacerle ver que la voluntad de los socialistas no es de ahora sino desde hace ya mucho tiempo le voy a relatar todos los instrumentos y medidas que se han puesto en marcha

en el año dos mil doce creación por parte del departamento de justicia liderado por la entonces consejera idoia mendia de un servicio de mediación hipotecaria que tenía como objetivo tratar de negociar con las entidades financieras las cantidades adeudadas por las personas afectadas y en última instancia

de las mismas medida pionera en el estado y que por cierto conoce perfectamente

que no sé si sabe usted quién es pero es una estrecha colaboradora

antes tan aplaudida por ustedes y ahora parece ser que tan denostada o no sé segundo a tal efecto también se suscribió un convenio de colaboración

y de censores jurados de cuentas que se mantiene en vigor

se aprobó una orden el día quince de octubre del dos mil doce por parte del entonces consejero de vivienda obras públicas y transporte el señor arriola le suena pues ese en el cual el registro de solicitantes de vivienda y los procedimientos de la adjudicación de vivienda de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico

exceptuar del procedimiento general de adjudicación de viviendas para destinarlas a las personas afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un lanzamiento en alquiler si se cumplían una serie de requisitos cuarto dieciocho de junio de dos mil trece se suscribe un convenio de colaboración

eudel un convenio que favorece

de casos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamientos de vivienda familiar y posibilitación de habilitar medidas para paliar estas cuestiones

directos entre los juzgados y los ayuntamientos directamente desde el juzgado a los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos atención

concreta a medida de cada uno de los afectados en fin yo creo que hay que diferenciar también muchas veces los casos

con otros casos en los que existe nula voluntad de hacer frente a las deudas existentes

que también los hay y que a través de este convenio también se detectan se ponen de manifiesto a los servicios sociales de cada municipio a día de hoy además del servicio de mediación hipotecaria tenemos

que adjudica directamente viviendas en casos extremos a personas que así lo necesitan y que van a sufrir un desahucio

por parte de aquellas personas que tienen algún tipo de problema y actúan de la mediación con este servicio es cierto que se ha detectado la conveniencia de que la detección de supuestos casos de vulnerabilidad sea más ágil que la actuación pueda ser más rápida más eficaz más eficiente pero eso no quiere decir que haga falta la creación

nosotros entendemos que eso no es necesario que tiene un coste adicional a los servicios que ya de facto se están prestando por parte de la administración además de una manera de la que creo que es ejemplar y que pone de manifiesto la eficacia que hay en la colaboración

entre las diferentes administraciones de euskadi y el consejo general del poder judicial y creo que además a favor de eso hemos realizado también medidas por qué

en la comunicación a los servicios sociales está perfectamente recogido todo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo que estaba recogido en su momento y que

del once de junio que modifica la ley uno barra dos mil en la que se establecían una serie de cuestiones una serie de itinerarios pero que se ha venido modificando para que desde

se comunique directamente a los servicios sociales de cada ayuntamiento en cuanto se detecta un caso de este tipo por tanto ya existe una obligación legal de comunicar a los servicios sociales obligación legal obligación legal a través de la ley además tal y como ha dicho usted en breve este gobierno llevará

la aprobación de un nuevo convenio con el consejo general del poder judicial y con la asociación de municipios vascos eudel que como decía anteriormente va a mejorar los instrumentos y va a mejorar los mecanismos para poder detectar con mayor celeridad y poder así actuar directamente con las personas afectadas

como decía y que además va a crear un nuevo registro informático para que la actuación interinstitucional también sea mucho más rápida y mucho más eficaz es decir una única aplicación sobre la cual poder trabajar y poder

que la aprobación de ese convenio es una prioridad para este gobierno como es prioridad también el desarrollo y gestión de aspectos urgentes que están pendientes de gestionar en relación a la ley de vivienda como es la aprobación del decreto que garantice el derecho subjetivo a una vivienda o como es por ejemplo

de más recursos para la ampliación del parque público de vivienda en alquiler a pesar de que ustedes no hayan querido aprobar los presupuestos a este gobierno

desde el grupo parlamentario socialista entendemos que ese ente que ustedes están proponiendo crear porque todos esos instrumentos todos esos servicios ya se están dando de manera eficaz probablemente no todo lo eficaz que a nosotros nos gustaría pero sí de manera muy eficaz muy eficiente muy directa y muy personalizada y que además entiendo que a través de la modificación de ese convenio con el consejo general de poder judicial y con eudel se va a mejorar sustancialmente

nosotros nos oponemos a la propuesta que traía bildu pero sin duda alguna nos encanta que ustedes

miles y miles de familias en situación de riesgo habitacional en euskadi

señora presidenta buenos días de nuevo a todos volvemos a debatir y a hablar sobre el tema de desahucios que evidentemente

en el que los ciudadanos se encuentran ante una situación como esta y es bueno dar

por el consejo general del poder judicial y que señalaban que durante el año dos mil dieciocho fueron causados más por la imposibilidad

así como hace diez años el ochenta por ciento de los lanzamientos tenía precisamente ese origen la imposibilidad de pagar la hipoteca ahora la situación ha dado la vuelta y la razón fundamental es no poder hacer

a los alquileres así en euskadi en el último trimestre del año pasado uno de cada cuatro desalojos que se llevaron a cabo se debió al impago de la cuota de alquiler por parte de los inquilinos se contabilizaron un total de doscientos treinta y uno sentencias judiciales que terminaban en lanzamientos

y el setenta y cuatro por ciento se debía precisamente

del alquiler lo cual suponía un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior de un seis coma dos por ciento mientras que los que se derivaban de no poder o de no querer pagar la hipoteca descendieron un cinco por ciento por qué doy estos datos porque evidentemente hay que tener en cuenta cuál es la procedencia

para en su caso poder hacer las modificaciones que fueran pertinentes es verdad que tenemos cifras altas que cualquier lanzamiento y la situación de vulnerabilidad que produce bueno para quien lo vive

las cifras de euskadi en cualquier caso también es verdad que algunas de las cifras que se dan en la justificación hay que matizarlas porque se habla

esos decretos son eso en muchos casos reclamaciones de pago que no conllevan

un decreto ese se dicta justo después de que se pone la reclamación judicial y que

lo primero que se hace es reclamar al dueño el pago de la renta reclamaciones que evidentemente deberán hacerse porque la solución

porque no se puede porque hay una imposibilidad económica y veces que no se paga la renta porque no se quiere y desde luego la solución no puede ser que no se reclame

pues cuál va a ser la consecuencia que se retraiga que no haya alquileres que se retraiga la oferta de vivienda y si no hay suficiente oferta

un incremento de los precios y esto no implica por si el señor martínez luego tiene tentaciones de decírmelo que no tomar medidas para evitar fraudes

un alquiler de temporada de lo que no es que no se puedan pedir fianzas de más de un mes que en ese caso en todo caso esa

creemos que todo esto tiene que controlarse pero también creemos que para controlar todas estas cuestiones ya existen instrumentos la solución debe de venir a nuestro juicio porque si la renta no se paga por falta de medios económicos los poderes públicos actúen para dar posibilidades a que se page esa renta o en todo caso para dar una solución habitacional a esa persona o a esa

una solución que nosotros compartimos que no es fácil pero y no seré yo precisamente la que más loas

esas soluciones que todo es mejorable evidentemente como se ha dicho aquí pero no creemos que afirmación que se hace precisamente en la justificación de que ha habido una relajación con relación al problema de los embargos no creemos que eso se corresponda con la realidad

como decía el señor andueza en euskadi ya contábamos con un servicio de mediación

y de la economía que mediaban entre las instituciones financieras en los casos de sobreendeudamiento familiar e impago de cuotas de la vivienda habitual para garantizar la consecución de las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda de los afectados este servicio de mediación constituía el eje central de ese servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar

el gobierno como se ha dicho aquí también en el año dos mil trece se firmó un convenio entre el consejo general del poder judicial y eudel que establecía un protocolo de actuación

en ambos casos de vivienda habitual y precisamente desde el momento

de esa resolución se pone en marcha todo el procedimiento para poder ayudar a esa

para atender las situaciones de especial vulnerabilidad en los procedimientos que pudieran desembocar en un desahucio es decir lo que decía la señora otamendi

de vulnerabilidad pues que se pongan en marcha todos los recursos para dar esa solución es cierto que ese convenio tiene ya unos años pero también es cierto como se nos ha dicho aquí

que en breve se volverá a firmar como se dice en la iniciativa y se ha repetido aquí tenemos también a kontsumobide

de abogados por lo tanto es cierto que en este momento existen distintos órdenes institucionales distintos departamento que se encargan de la información y actuación en materia

imprescindible la coordinación de todos ellos y una actuación conjunta pero para esa coordinación es necesario crear un organismo más de verdad yo no veo que la solución sea crear ese organismo y que eso vaya a solucionar la cuestión creo que todo los contrario que lo puede

entonces se crea lo que aquí se creó hace tiempo porque si se crea este organismo entonces van a desaparecer

otros organismos se le van a quitar competencias a otros organismos que están en actuación en este momento porque ustedes piden la creación del servicio unificado

servicios y recursos disponibles entonces en el punto dos dan una serie de funciones entonces esas funciones qué son las que tendría esa oficina de intermediación

el departamento de vivienda entonces cuáles serían las funciones de ese servicio unificado no las acabamos de ver yo no iba a ser

sobre todo si esos nuevos chiringuitos como es en este caso no vienen a aportar nada sino a nuestro juicio

todo lo contrario porque lo único que viene a generar es duplicidad

haya dicho que ese nuevo servicio va a ser barato nosotros lo que creemos es que va a detraer recursos

que realmente tienen que ir dirigidos y es precisamente

a quien con sus propios medios no pueda satisfacerla y ese es el objetivo principal a nuestro juicio de los poderes públicos lo hemos dicho en muchas ocasiones esa satisfacción de la oferta de una vivienda en alquiler debe de ser responsabilidad de las instituciones públicas bien sea mediante la construcción

el departamento de vivienda pero desde luego lo que no se puede es pretender trasladar a los propietarios privados dicha obligación y

mediante el canon mediante la expropiación el alquiler forzoso etcétera el aumento de esa oferta

y por lo tanto una disminución de la litigiosidad por ello

este servicio de mediación como si fuera la panacea para la solución de todos los problemas

que no de inicio creemos que la creación de un organismo nuevo no es la solución que en euskadi ya existen instrumentos suficientes que lo que se trata es de coordinar efectivamente dichos instrumentos y que las instituciones que tienen las posibilidades de poner en marcha esos instrumentos

dicha actuación pero este organismo no es necesario el gobierno vasco que es el competente en materia de vivienda es el que puede y debe hacerlo muchas gracias eskerrik asko

vale pensaba que estaba en el parlamento vasco y no en un plato pero estamos en un plato

y de la señora llanos yo he hecho una proposición no de ley

en la que pide crear un organismo público que evidentemente como todos los organismos públicos tendría su reglamentación basada en la ley

laboral ustedes dos han llamado eso chiringuito chiringuitos son fundaciones que se hacen ad hoc como

para tener a sueldo a un líder ultra son asociaciones que en este país país vasco se crean asociaciones cercanas a los partidos del poder en distintas en distintas áreas que perciben subvenciones directas sin pasar por concurrencia pública eso son chiringuitos

digo si vamos a jugar a esa descalificación barata pues bueno pues jugamos a esa descalificación barata pero esos son chiringuitos esto es una propuesta mejor o peor yo ahí no me voy a meter y señora llanos cuando yo no lo planteaba como la solución mágica lo planteaba como una más y una solución que podría ayudar y ahí en esos términos vamos a debatir pero de chiringuito pues sinceramente

son otras cosas que en este país sabemos mucho de ellas pero no un organismo público

eso no es un chiringuito y luego lo de no sé yo creo que hay un tic o una alerta o no sé algo que

sale fraude pero nadie está negando en esta iniciativa nadie está negando que haya determinadas personas concretas que puedan hacer las cosas mal aunque yo sea

general en su primera vivienda el noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de los casos quiera pagar

pero precisamente si leemos el punto el punto dos para tranquilizar esa alerta de determinados dirigentes políticos que hablamos de derechos sociales de derechos de la ciudadanía fraude ya saben cuál es el dato por ejemplo del fraude en la rgi menos del uno por ciento ya vale de esos discursos punto dos de la pnl y de la transacción

habitual y en particular situaciones de sobreendeudamiento restructuración de deuda hipotecaria

esta iniciativa vaya a pretender que se perpetué una cosa o la otra no estamos hablando de mediación y lo que pretende la iniciativa para bien o para mal

no lo voy a negar el resto de los argumentos en mi opinión sí lo que unificar unificar servicio que el departamento de vivienda del señor arriola por lo menos hasta la siguientes elecciones lidere esto

situaciones de descoordinación que pasan quizás no es la solución pero tampoco han planteado otra más que seguir igual eso es el debate que estamos planteando seguir igual o soluciones innovadoras lo del convenio estamos de acuerdo si lo firmamos en el monográfico no hace falta

lo que ya hemos aprobado y señora

habrán bastado nuestros argumentos cuando ha habido algún grupo parlamentario que ha reusado al uso de su turno de réplica señor martínez

nos gusta los platos pregúntele por los platos al señor iglesias que sabe un rato

mucho más de chiringuitos que el señor iglesias de platos

más rápidos y más eficaces que el que tenemos ahora mismo con ventanilla única la que tenemos en casi todos los ayuntamientos de euskadi

en su primera intervención me ha dicho que cuando al partido socialista nos ponen a elegir entre personas y mercado elegimos mercado mire resulta curioso no en

que sabrá de sobra que el pasado día veintidós de enero se debatió en el congreso de los diputados una propuesta un real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler y su voto unido a eso que dicen ustedes que reúsan tanto de los derechos sociales el partido popular en este caso y ciudadanos su voto contrario

no pudiera aplicar una serie de medidas y con su no con el no de podemos dijo no a la ampliación de la prórroga obligatoria del contrato de alquiler a cinco años en lugar de los tres actuales y la prórroga tácita del mismo que se eleva de uno a tres años ustedes dijeron no a la limitación de las garantías adicionales a su máximo de dos mensualidades

a que el arrendador sea quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato siempre que sea una persona jurídica salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario ustedes dijeron que no a facilitar

para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato sin esperar como hasta ahora a que finalice ustedes dijeron que no a no tener que repercutir de forma obligatorio el ibi al inquilino del alquiler social ustedes dijeron que no

contenidos en el real decreto para que se paralice los desahucios hasta que se encuentre una alternativa

o familias vulnerables ustedes dijeron que no a la modificación de la ley de propiedad horizontal prevista en el real decreto para permitir por una mayoría cualificada de tres barra cinco

así como que dichos apartamentos deban aportar más a los gastos comunitarios aunque con un límite de un veinte por ciento ustedes dijeron que no

destinarlo a promover su parque de vivienda pública y poder establecer una bonificación de hasta el noventa y cinco por ciento

a precio limitado a precio limitado y ustedes dijeron que no a estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la flexibilidad modificando la ley

para aumentar en un plazo de tres años al diez por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios y establecer la posibilidad

en materia de accesibilidad y nosotros somos los que décimos que no a las personas nosotros somos los que damos la espalda a las personas y a aquellas familias más vulnerables pues sí

que nunca he sido creyente de inicio yo no soy creyente pero haciendo un análisis de las enmiendas que ustedes presentaron al presupuesto que posteriormente rechazó el gobierno porque no tenía los apoyos necesarios he encontrado una enmienda suya cuyo objetivo

en materia de emergencia habitacional es decir lo que ustedes han traído aquí

que ustedes para la creación de un servicio unificado que ustedes dicen que es merke merke destinaban ciento ochenta mil euros

se puede hacer algo ustedes creen que con las condiciones que están proponiendo conjuntamente con estos señores en la ley de función pública

de poner en marcha un servicio como este una oficina unificada y además que los funcionarios que trabajan en la misma tengan unas condiciones dignas de trabajo si ustedes lo consiguen créanme

no me puedo resistir porque es verdad que el señor martínez y luego me referiré a él sí que

nos ha intentado aunque luego en su segunda intervención ha dicho que no mostrar como panacea

también el señor andueza ha intentado a través de

ver a todo aquello que ustedes habían dicho que no al no convalidar ese decreto que también

la solución al problema de vivienda en españa y porque

revolucionar las soluciones a la vivienda que iba a solucionar los problemas urgentes de vivienda social y protegida ahora eso sí en ese decreto la mayor parte de las iniciativas que se planteaban afectaban

eran un conjunto de medidas aisladas sueltas que daban solución a algunos problemas pero que no iba al meollo de la cuestión
isiltasuna mesedez en todos los segmentos y en la falta

jurídica por qué se rechazó ese decreto por lo menos por parte de nuestro grupo pues porque en el tiempo de vigencia en el mes de vigencia que estuvo el decreto

de los arrendadores en vista de si se aclaraba y si se despejaba la normativa aplicable porque

pues el mercado se retrae y es que ustedes todo lo solucionan con medidas intervencionistas

y para incrementar la oferta hay dos opciones básicas o se hace más vivienda nueva

en absoluto en absoluto y desde luego

seguridad jurídica para los inquilinos sí pero será jurídica también para los propietarios para que se pongan viviendas en el mercado y hablaba usted señor martínez de buenismo mire yo le voy a decir dos cuestiones una en los juzgados gente que no paga porque no quiere

así así pero yo eso no lo voy a tener en cuenta ni lo he tenido en cuenta a la hora de arbitrar la solución que tenemos que dar

porque es verdad que es un problema grave y que las cifras están ahí pero con que hubiera una familia una o dos que tuvieran un problema de no tener una vivienda los poderes públicos debemos actuar yo dejo totalmente al margen eso que no es cuestión de ser buenista o no es cuestión de que la realidad está ahí y que existe y usted me decía

por qué le decía yo mire lo de los chiringuitos lo he dicho siempre

lo que no vale señor martínez y se lo ha dicho el señor andueza pero es que yo lo tenía lo mismo lo que pasa que como ha hablado antes que yo el señor madrazo de chiringuitos sabía

es que cuando uno propone un organismo es un organismo con buena voluntad

y cuando esos mismos organismos lo propone un gobierno de otro color distinto entonces es un chiringuito no oiga si es un chiringuito es para los propios y para los ajenos y esto

pero es destinar fondos a un organismo a nuestro juicio innecesario es necesaria la coordinación sí es necesario

sí es necesario detraer fondos de la política de vivienda para crear un nuevo organismo quito la palabra que no le gusta no en absoluto y por eso
vamos a votar en contra de la iniciativa eskerrik asko llanos

al pleno de este parlamento vasco un tema desde luego para nosotros crucial y desde luego creemos que también crucial para la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos como es

que se ponen en marcha por parte del gobierno vasco

incluso señalar que creemos y lo digo honestamente y lo voy a tratar de argumentar a lo largo de esta intervención que en esta materia concreta

a todos los ciudadanos vascos y por qué digo esto y por qué el partido popular afirma con rotundidad lo que acabo de decir esta es la cuarta interpelación que formula este grupo a lo largo de esta legislatura

la cuarta interpelación y en este caso preguntando

de momento por lo menos no esté en este debate no sé si lo estará siguiendo en algún despacho si se planteaba

y apostar de una vez por todas por políticas por medidas que realmente sean efectivas

de las familias vascas desde luego la respuesta de la consejera tenemos que decir y lamentar que fue un nuevo ejercicio de escapismo y que desde luego

corta en relación a los compromisos que este gobierno además había adquirido en su programa de gobierno y en relación también a los compromisos con el partido popular

de dos años por eso queremos afirmar claramente que las familias vascas no están en la agenda política de este gobierno

no es una prioridad para este gobierno argi eta garbi adierazi nahi dugu gaur ere debate honetan familia politikak

para implantar medidas de apoyo a las familias es que la estrategia de apoyo a las familias la pasada legislatura en el pleno de política general del dos mil quince el lehendakari nos dijo que iba a llegar próximamente estamos hablando de la pasada legislatura en el año dos mil quince bueno pues

se aprobó con dos años y medio de retraso tenemos que decir claramente que también se han incumplido las inversiones comprometidas

porque el gobierno vasco está muy acostumbrado a hacer anuncios que ocupan páginas de periódicos

eso sí en plena campaña electoral precampaña electoral mejor dicho porque fue en

se supone que cincuenta millónes de euros más cada año cada ejercicio presupuestario que desde luego en esta cámara y en los presupuestos que se han presentado no se han visto pero es que el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias también llegó con retraso señorías es que el tercero acababa su vigencia en el dos mil quince y este se aprobó el pasado verano el diecinueve de julio del dos mil dieciocho es decir todos los instrumentos necesarios porque constituyen el marco

han llegado tarde por la inacción y la pasividad de este

y claro decía retrasos en los cumplimientos adquiridos por el gobierno vasco en la puesta en marcha de ayudas concretas este gobierno

y que ocupan titulares y que además se anuncian cuando la oposición plantea aquí iniciativas concretas

pero este gobierno anuncia y propone como una de sus medidas estrella en política de familia que se incrementaría la ayuda

esta legislatura pues esta ayuda también ha llegado tarde por la inacción de este gobierno en aprobar el decreto correspondiente que se aprueba el verano pasado es decir en el dos mil dieciocho las familias vascas en relación a esta ayuda el dos mil diecisiete en blanco pero es que hay que decir más es que con esta ayuda que se pone en marcha en el dos mil dieciocho con efectos retroactivos porque ya era para caérsele al gobierno la cara de vergüenza

es que vamos absolutamente tarde en relación a las medidas que este gobierno se comprometió a poner en marcha ya en el tercero plan de familia estoy hablando de una ayuda que ha llegado en el año dos mil dieciocho que tenía que haber sido una realidad para las familias vascas en el año dos mil catorce

de este gobierno para esta legislatura se anuncia casualidad también

la consejera nos anuncia concretamente el veintiuno de marzo que se va a arbitrar y nosotros creemos que es una buena noticia y una buena medida por eso en las enmiendas que presentamos a los presupuestos

hecho siempre con todas las partidas que han ido destinadas a las ayudas a las familias siempre hemos pedido su incremento

no ha sido capaz de ejecutar las cantidades que tenía consignadas en los presupuestos nuevamente por su incapacidad y su falta de un compromiso real con la política de familia

para las excedencias por paternidad durante las doce semanas en los doce meses posteriores al nacimiento

y con una cuantía equivalente al cien por ciento de la base de cotización pues esta medida la anuncia la consejera

porque la anuncia tal cual como la acabo de señalar y se puede comprobar el diario de sesiones del pleno celebrado monográfico ese día sin ningún tipo de límite

llega la comparecencia de presupuestos de este año del dos mil diecinueve

y nos dice a preguntas de este grupo que en el mejor de los casos

se aprobaría en otoño del diecinueve que no iba a ser para los primeros hijos sino a partir del segundo hijo y que encima no iba a tener efectos retroactivos

no me digan señores que este gobierno adolece claramente de una falta de compromiso y de

en relación al cumplimiento de las propias medidas que anuncia esta medida se anuncia como decía el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho y no se va a poner en marcha en el mejor de los casos hasta como decía

este año en otoño por no decir

de ejecución de las partidas presupuestarias es que este gobierno tiene dinero es que si nos vamos a la ejecución de los presupuestos del dos mil diecisiete

treinta millónes de los sesenta y tres millónes todas las ayudas por nacimientos por conciliación se ejecutan cuarenta y ocho millónes de euros señorías es que yo no sé cómo a este gobierno no se le cae la cara de vergüenza cuando habla de políticas de familia y cuando aquí viene a hacer anuncios

que como vemos llegan tarde y mal y los ciudadanos vascos desde luego no se pueden beneficiar pero es que luego la señora consejera nos dice en la respuesta a la interpelación que le formulamos que es que hay otros países como francia que hace tiempo que se han puesto las pilas

de europa que hace tiempo consideraron que este tema era una prioridad y lo pusieron en la agenda política como uno de los principales cometidos a desarrollar

cuando este gobierno ha tenido herramientas ha tenido el dinero y ha sido incapaz de medidas concretas para favorecer a las familias vascas es que tenemos un problema estructural de natalidad es que las familias en todas las encuestas y en todos los estudios

concluyen lo mismo que las familias no tienen los hijos que desean que las familias tienen dificultades para independizarse los jóvenes tienen dificultades para

y este gobierno cruzado absolutamente de brazos por eso hemos presentado esta moción quiero decir que volvemos a hacer hincapié

se pueden ejecutar las cantidades que están consignadas presupuestariamente y que además el partido popular con un compromiso real y sincero con las políticas de familia en las sucesivas enmiendas las incrementa año vemos que esos compromisos el gobierno vasco los incumple hemos pedido un incremento de las cuantías y de los años de estas ayudas me estoy refiriendo a las ayudas por nacimiento y a las ayudas por la conciliación pero en relación

en esta tribuna por la consejera cuyo decreto no se va a aprobar hasta el mejor de los casos en el dos mil diecinueve no va a tener efectos retroactivos y va a abarcar solo a partir del segundo hijo

fue general nosotros queremos que se cumpla el compromiso que aquí anunció la consejera en esta misma tribuna y lo que pedimos

y que se dé desde el primer hijo es que hay dinero señorías es que vemos que este ejercicio el gobierno vasco va a tener seiscientos millónes de euros más que viendo los planteamientos que se han hecho

de prórroga presupuestaria se va a gastar trescientos millónes de euros que habrá que gastárselos me parece muy bien en subida de sueldos pero es que este gobierno según lo que hemos visto se va a gastar quince millónes en subir

y se va a gastar de forma absolutamente raquítica dos millónes de euros en quitar el recorte del cinco por ciento ese recorte que viene de la etapa de patxi lópez y que tanto criticó

ahora se va a quitar pero no se puede hacer un mayor esfuerzo inversor cuando hay dinero

pero no se puede ni mentar las cuantías pero no se puede poner en marcha esa excedencia ya desde el primer hijo y con efectos retroactivos

dónde están las familias vascas para este gobierno a parte consideramos importante

que se impulsen también y en la línea del debate monográfico que tuvimos y de propuestas concretas que puso el partido popular encima de la mesa todas las medidas que tienen que ver

de que hay que eliminar la brecha salarial pues aquí tienen una propuesta concreta para eliminar la brecha salarial

diferencias que existen y la desigualdades que existen también en los distintos

ayudas a las empresas para que fomenten planes de conciliación otra medida otra medida tenemos una página web concilia

apoyo en materia de conciliación a las empresas las empresas nos dicen que es una herramienta que no les sirve vamos a ponerlas en marcha que el gobierno vasco tenga el interés

para asesorar a las empresas en materia de familia señorías creo que

es cero creo como he dicho anteriormente que las familias

con medidas concretas no son una prioridad para este gobierno instrumentos que son el marco para poner en marcha medidas concretas que han llegado tarde

compromisos que llegan tarde y son insuficientes y este gobierno por su inacción es incapaz de ejecutar

para ayudar a las familias vascas creo que se lo tienen

importante y que no lo haya considerado así por no estar en estos momentos presente

para nosotros son absolutamente insuficientes señora

cuando quiera pero creo que hoy estamos hablando de propuestas concretas creo hoy que se trata de visualizar nuevamente la pasividad de este gobierno

creo que cuando usted habla de que se impulse medidas multisectoriales integrales integradas

y nosotros hubiéramos estado dispuestos a hablar de otras medidas si usted las hubiera puesto encima de la mesa
y la otra enmienda que se ha presentado por parte del partido nacionalista vasco tengo que decir que es claramente insuficiente amaitzen joan

nada de ambición absolutamente continuista y claro nosotros no podemos avalar una política continuista que desde luego que creemos que adolece y que tiene muchos déficits y que desde luego no es adecuada en absoluto
para dar un impulso a las políticas de familia en el país vasco eskerrik asko garrido

egun on berriz ere el título de la iniciativa que estamos debatiendo es relativo a dar un giro a las políticas de apoyo a las familias vascas

respuesta a más familias para que sean más amplias para que brinden soluciones a la diversidad de arreglo familiares que hay en la sociedad vasca de dos mil diecinueve y para ello

entendemos que se deben ampliar y reforzar los apoyos económicos sin duda pero también que se tienen que impulsar otro tipo de medidas y soluciones

proponemos en nuestra enmienda o como las que propusimos en el debate monográfico que hubo en esta cámara cuando vimos el título de la iniciativa teníamos una franca curiosidad llegamos a pensar que habría presentado algo realmente ambicioso sin embargo una vez leída y señora garrido no me lo tome a mal más de lo mismo

parece que el partido popular a través de esta iniciativa quiere sacar el listado

legítimo sin duda pero no políticas transformadoras

demandando que se le dé más dinero a las familias cosa que siempre suena bien pero sin decir ni pio sobre las causas que provocan que las familias tengan tantas y tantas dificultades para conciliar es por ello que en nuestra opinión la moción original de hoy no presenta demasiadas soluciones y desde luego

política el grupo popular le reclama en su moción al gobierno que continúe impulsado un modelo de políticas de apoyo a familias que consiste básicamente en dar ayudas económicas

y resuelvan como buenamente puedan la maratón de fondo que supone mantener la actividad laboral hacer carrera profesional cuidad de familiares dependientes cuidar de hijos e hijas tener una vida personal mínimamente satisfactoria

nosotras cada vez más repetimos que defendemos los apoyos económicos pero que solo

los apoyos económicos los defendemos además cuando son derechos no cuando son dadivas de un gobierno o de un pacto de turno

por eso queremos que todas las prestaciones económicas estén sin recorte todas porque digo yo que alguna familia también se verá afectada por los recortes de la rgi pero bueno además de esto nosotras creemos que las políticas de familia tienen que ir más allá

pero para ello en nuestra opinión es indispensable que se abran

para que haya otras soluciones yo le tomo la mano con ese ofrecimiento de debatir cuando quiera pero que podamos tener oportunidad de hacerlo nosotras ponemos sobre la mesa una enmienda

que hacen cada vez más dependientes a las familias de las decisiones de los gobiernos que reproducen roles de género que no transforman y que además visto los presupuestos

no se gasta el dinero en nuestra enmienda proponemos sí aumentar diversificar y rediseñar

pero también para que no solo sean las mujeres las que se hagan cargo de los cuidados no sé si ahí entiende usted que eso no tiene que ver con las familias hay que decir señora

bastante en nuestra opinión al menos de perspectiva de género y demuestra eso también poco interés en los derechos de las mujeres que son las principales malabaristas y cuidadoras

usted propone hoy reproducir la misma política que tenemos con más dinero a día de hoy la señora garrido y la señora

nueve de cada diez ayudas para la conciliación son solicitadas por mujeres en consecuencia solo son las mujeres las que están saliendo del mercado laboral eso contribuye al techo de cristal

a que la brecha salarial se haga más grande así que señora garrido si se aumenta la cantidad y no se revisa el diseño de esas ayudas gracias a ellas entre las parejas heterosexuales tendremos cada vez más mujeres fuera del mercado laboral dedicadas a los cuidados y perdiendo oportunidades de tener una autonomía plena o por lo menos

alejados de los cuidados familiares mejorando las condiciones laborales y accediendo a puestos de decisión luego

nosotras no es eso lo que queremos mantener entendemos que si ustedes quieren modificar esta situación tendrán que empezar a prestarle más atención a los derechos de las mujeres

desde elkarrekin podemos además de más y mejores ayudas económicas que no se lo niego queremos que se transforme la forma en la que nos organizamos como sociedad queremos avanzar

se coloquen las vidas en el centro de un modelo de desarrollo humano y sostenible porque el modelo actual el que defiende el partido nacionalista vasco pero también el suyo señora garrido

e insisto en particular sobre las mujeres que son imprescindibles para que todas las personas tengamos

yo coincido tengo que decir con la señora garrido toda la crítica que ha hecho a los anuncios reiterados de lo mismo que luego no llega a ninguna parte en la búsqueda de soluciones que no sean cortoplacistas paternalistas o electoralistas nosotras proponemos que se abra un proceso

en el tiempo que nos ha tocado tenemos entre manos la oportunidad y el desafío de dar a los cuidados y la sostenibilidad de la vida el lugar que le corresponde

darles una respuesta a la altura sería sí un salto cualitativo y sin precedentes y por eso esta es la base de nuestra proposición y por eso

un tanto miope retomamos además de forma concreta y clara acuerdos que ya se han alcanzado

se ha cumplido apostamos también por trabajar por los permisos parentales iguales e intransferibles y pagados al cien por ciento también en el ámbito privado

claro que sí pero también proponemos que se impulsen servicios de apoyo

que vayan más allá de las ayudas económicas sabe usted cuánto tardan en resolver las ayudas económicas a día de hoy se lo pregunto me lo responde en la réplica y ya luego seguimos hablando nosotras entendemos que la corresponsabilidad involucra

nosotras entendemos que también tiene que involucrar al estado y a las empresas del ámbito privado por eso incluimos un punto que las llama

queremos que la reproducción social y la sostenibilidad de la vida dejen de ser un maratón de fondo con obstáculos para familias y una carga pesada solo sobre nuestros hombros los de las mujeres

en lo que las administraciones públicas están ausentes queremos que la conciliación deje de ser un problema privado y pase a ser una responsabilidad pública queremos

se generen las condiciones necesarias para que las familias sean espacios donde potenciar vidas dignas plenas proyectos sueños encuentros corresponsabilidad protección queremos que esos cuidados que están en el centro de este discurso estén también en el centro de las políticas públicas y en el de los intereses económicos no nos olvidemos de esa parte

es por ello que hoy vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y en nuestro voto nos vamos a abstener nos vamos a abstener pero no vamos a dar el apoyo

más apoyos económicos pero que esté claro que nuestra apuesta prioritaria es la defensa de los servicios integrales de los servicios públicos de los servicios de calidad y para toda la ciudadanía

de la infancia del derecho al cuidado de todas y de todos unos servicios para una sociedad que ponga de verdad las vidas en el centro argi eta garbi utzi nahi dugu

debatimos en este punto del orden del día sobre políticas de apoyo a las familias vascas pero sin embargo esta iniciativa es muy similar

anterioridad una de ellas el nueve de marzo y el dos de noviembre del dos mil diecisiete y la última

sin embargo mi grupo parlamentario los socialistas vascos consideramos que esta iniciativa vuelve a reiterar de nuevo la última presentada sin tener en cuenta

hemos debatido en el pleno monográfico sobre familia el veintiuno de marzo del año pasado donde se acordaron numerosas resoluciones

y donde tuvimos la oportunidad de debatir en profundidad sobre las medidas a adoptar en apoyo a las familias en nuestra comunidad autónoma

con anterioridad al monográfico ya se contaba con la estrategia vasca de inversión en las familias y la infancia en el último cuatrimestre del dos mil diecisiete

que la aprobación del documento definitivo se retrasó porque se consideraba que

porque los réditos de estas estrategias se consiguen con el paso de los años y eso exige una estrategia global que no cambie cada poco tiempo y

del tiempo permitiendo así mejoras en la tasa de natalidad

dando importancia como he dicho a la participación dentro de la misma del tercer sector de patronales sindicatos y otras organizaciones y también de la importancia

y social y dentro del ámbito laboral también especialmente dentro de las empresas y durante el último cuatrimestre del dos mil diecisiete

se llevó acabo esa participación y se elaboró el documento definitivo se firmó el pacto vasco de familias y la infancia el dieciocho de enero del dos mil dieciocho con el apoyo

y todo ese proceso culminó en junio del dos mil dieciocho con el cuarto plan de apoyo a las familias y la infancia cuya es de dos mil dieciocho dos mil veintidós donde se materializó la estrategia y el pacto en medidas concretas así como se tenían en cuenta resoluciones

también se ha aprobado el verano pasado la modificación del decreto de ayudas de nacimiento de hijos

del dos mil dieciocho se han cumplido con eso las medidas y los compromisos asumidos y firmados en la enmienda transaccional que se aprobó en febrero

popular no podemos olvidar que euskadi es la única comunidad autónoma que va ya por el cuarto plan mientras que en otras comunidades autónomas

todavía y que además en esta comunidad autónoma las partidas económicas destinadas

son las mayores del estado si el año dos mil dieciocho se asignaba en presupuestos para ayudas de conciliación y nacimientos cuarenta y siete millónes de euros como dijo el otro día la consejera

en el año dos mil dieciocho tuvimos asignados sesenta y nueve millónes y medio y teníamos incluidos dentro del presupuesto del año dos mil diecinueve setenta y nueve millónes de euros para estas ayudas su grupo político señora garrido

la consignación realizada para el dos mil diecinueve para estas ayudas

los presupuestos del dos mil diecinueve no tendríamos este problema verdad señora garrido por otra parte en su intervención el día de la interpelación señora garrido usted pedía que se aplicara el incremento de ayudas para el ejercicio dos mil dieciocho de una

aunque fueron advertidos desde el principio de la negociación de que no habría suficiente demanda de las mismas sin embargo

y luego cuando ha visto que efectivamente ha sido así vino

al gobierno y dijo que podían haberlo modificado o cambiado reconozca que no lo plantearon ustedes bien pero vemos además que el grupo popular nos vuelve a plantear el debate centrado asistencialismo fundamentalmente sin embargo nosotros consideramos

que nuestro objetivo tiene que ser la universalidad y contar con una estrategia integral

original suya y vamos a apoyar en este la enmienda a la totalidad firmada por el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista porque plantea medidas que aprovechando que hoy debatíamos de nuevo sobre familia pueden servir para avanzar en la universalidad

al que antes he hecho referencia y dentro de la misma se recogen medidas como que el parlamento vasco inste al gobierno a que dentro del plazo temporal el que esté

plan de apoyo a las familias y la infancia se

para reorientar las actuales ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral y a personas trabajadoras que se encuentren en situación de reducción de jornada al objeto de garantizar la cobertura económica de las

por paternidad o para el cuidado de hijos en el caso de familias de situaciones de especial necesidad modificando el decreto de veintinueve de junio de dos mil diez

al objeto de introducir de una forma gradual una prestación económica para la cobertura de las excedencias para el progenitor no gestante

y en un periodo distinto al permiso de maternidad con una ayuda equivalente al cien por ciento de la base de cotización mejoras graduales también en las prestaciones económicas periódicas por hijo e hija a cargo planteando una modificación del decreto de doce de marzo del dos mil quince

teniendo como objetivo ampliación de las ayudas de los segundas hijas e en una tercera anualidad ampliación del concepto de hijo o hija para incluir a los mayores de dieciocho años y menores de veinticinco que viven en el domicilio

cambiar la fecha para el inicio del cómputo del plazo de presentación de solicitudes iniciales en el caso de adopción y tutela y consideración de la anualidad correspondiente a la adopción entre otras medidas también incluye impulsar el desarrollo de desarrollo de proyectos piloto y planes de conciliación de la vida laboral familiar y personal en las empresas mediante por ejemplo

de conciliación establecer una línea de subvención específica para la financiación de estos planes de conciliación en las empresas y también

de conciliación realizar campañas de sensibilización y promoción de esas medidas de conciliación con una forma de beneficio compartido e impulso de esa página web concilia para configurarla como herramienta efectiva de apoyo

impulsar la creación de un grupo de trabajo interinstitucional en el marco del órgano de coordinación tributaria para analizar las posibilidades de gestionar

y las deducciones fiscales por descendientes no podemos hacer solamente políticas que se ha demostrado que no funcionan por sí solas cortoplacistas

con medidas que ayuden a cambiar tendencias como las medidas que hemos propuesto en nuestra enmienda a la totalidad el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista

que voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad

y bienvenidas sean las mociones y si es caso hasta las elecciones

como eje vertebrador de la vida política el problema radica en cómo se enfocan esas mociones esas iniciativas parlamentarias y permítame señora garrido

ha planteado usted esta moción de una manera parcial sesgada

como si fueran suyos y mediante el discurso habitual querer colarnos el tema de la retroactividad en la línea marcada por algún agente importante del sector del que normalmente se suele erigir usted como ariete político y querer dar así la impresión de que lidera lo que lidera

y no lidera porque con esa visión parcial enfocada únicamente al dinero al incremento de las cuantías económicas solamente a la visión únicamente económica solo se pueden liderar intereses pero no una política real destinada a afrontar de una manera transversal y absolutamente central un reto de esta magnitud de manera que finalmente abarcar tantos temas porque tantos temas tienen cabida en esta materia que la iniciativa las respectivas enmiendas incluso las propuestas de transacción se acaban pareciendo más a un programa electoral o a las tablas de moisés y acabamos descentrando el tema guk

muy curiosa con usted señora guanche y le aseguro que no soy el único

siempre me parece que hay posibilidades de llegar a un acuerdo pero a la postre siempre sucede

media algún abismo insuperable hasta este momento y en ese sentido

de modo que dispongan de oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida y familiares plenamente con la diferencia de que yo creo que se hace y se está materializando en este cuarto plan de apoyo a las familias sobre el cual podríamos debatir

todo lo que se necesite debatir al igual que lo que señala en su punto cuarto cuando dice

la perspectiva de género en los tipos de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas

y no reproduzcan estereotipos exclusión ni discriminación por motivos de género u otras relaciones o asimismo con los puntos ocho y nueve de su enmienda que

en todo caso en cuanto al sistema vasco de cuidados que usted proponía mire nuestra opinión no es contraria a esa posibilidad

y en ese sentido creo que al objeto de visibilizar los cuidados y los esfuerzos que recaen sobre las familias y en particular sobre las mujeres

en el primer punto de su enmienda deberíamos de empezar por cuidar a las cuidadoras en este caso

comenzando por un estudio compartido con un diagnóstico potente donde se pueda valorar la necesidad de ese sistema porque cómo se plantea un sistema si no hay ni estrategia ni diagnóstico ni reflexión ya que usted hablaba de impulsar un estudio

habrá que empezar por el diagnóstico y estudio compartido en torno a una estrategia de personas cuidadoras para llegar

y tampoco por obligación a ese sistema vasco de cuidados al que usted se refería

usted estimó que quitaba lo añadido a su enmienda original y creo que con eso

por cierto hablando de valor añadido no parece que aporta mucho el proponer como hace usted el su punto quinto el acceso gratuito al consorcio de haurreskolak

por la señora consejera de educación desde noviembre o diciembre

plano askoz ere zabalago batean jarri duela eztabaida ha salido el tema del sistema de cuidados y no me puedo resistir a que salga esto para mí algo muy parecido al sistema de cuidados ya lo tenemos y es el sistema de servicios sociales

con fundamento con ese compromiso que ha manifestado aquí el señor urrutia y con que además se aprovechara ese sistema se servicios sociales para generar empleo de calidad y no para para generar precario

de igualdad de cuidados y de todo esto que hoy estamos planteando

izan genuenean gai honi buruz señora guanche yo creo que es momento de la concreción ya llevamos dos años de legislatura por lo tanto creo que no es el momento y sinceramente cuando tenemos propuestas concretas encima de la mesa yo creo que ya es hora de descender

sobre todo cuando este gobierno ha hecho anuncios y sobre todo cuando hemos visto que estos anuncios claramente han sido incumplidos por eso creo que ya tuvimos ocasión de debatir ampliamente

sobre esta cuestión en el debate monográfico y que ahora era el momento de descender yo no solo me he centrado en tema de la ayudas y si me he centrado en el tema de las ayudas es porque el gobierno y en la propias intervenciones de este gobierno y de la propia consejera y en la respuesta que me dio en la interpelación ella puso el foco en las ayudas por nacimiento es que cuando hablaba expresamente

decía que otros países que tuvieron este problema empezaron a adoptar medidas en el ámbito de la natalidad después de la segunda guerra mundial como fue francia y trascurridos cuarenta años en este momento está viendo los resultados por lo tanto ella cuando nos

no solo obviamente las ayudas por nacimiento pero que son una parte muy importante

y para que las familias en definitiva pueden desarrollar el proyecto de vida

me decía lo de la resolución de la ayudas pues usted y yo sabemos que desde luego el tiempo

se alarga en el tiempo los meses de resolución de las ayudas pero también hay que recordar que este gobierno ha habilitado más recursos precisamente con el objeto

a estas ayudas y era un compromiso que especialmente además adquirió con el grupo popular y voy otra vez a referirme al tema de las ayudas porque también lo trajo a colación la propia consejera es que la propia consejera

porque había ido aumentando el presupuesto señorías decía que en el año dos mil catorce que hay que recordar que en ese año además las ayudas a la conciliación se recortaron a la mitad

en el dos mil quince sesenta y nueve millónes de euros y en el dos mil diecinueve setenta y nueve millónes de euros presupuesto de ayudas nacimiento y conciliación

tuvimos un presupuesto de sesenta y tres millónes de euros y este gobierno ejecutó cuarenta y ocho millónes de euros es decir a este gobierno al gobierno del partido socialista y el partido nacionalista vasco

porque luego ha sido incapaz de aprobar los instrumentos necesarios para poner en marcha esas medidas y ha sido incapaz de aprobar los decretos que dan soporte a esas medidas concretas como me estoy refiriendo al decreto que se aprobó en verano

hijo de dos a tres años o me estoy refiriendo al decreto famoso de las excedencias que se anuncia el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho

hasta otoño del dos mil diecinueve y encima no se va a dar cumplimiento al compromiso adquirido por la propia consejera que se dijo

efectos retroactivos por lo tanto creo que es evidente gobierno no le importan las familias vascas es que lo que no me puede decir la consejera es que los presupuestos han incrementado

por cierto y todo hay que decirlo a propuesta del partido popular que

encima de la mesa más recursos y por cierto también hay que recordar

hubieran ya previsto en relación al cumplimiento de los compromisos con el partido popular eliminar el recorte del siete por ciento a lo largo de esta legislatura y lo hubieran previsto en los presupuestos que presentaron en noviembre del dos mil dieciocho que no lo tuvieron presente porque no venía la eliminación de ese recorte viene ahora pero es absolutamente insuficiente poner dos millónes de euros

cuando ustedes mismos consignaron una cantidad de diecinueve millónes de euros para las excedencias es que ustedes este mismo año se lo van a pasar en blanco como se pasaron el año dos mil diecisiete con el incremento de la ayuda del segundo al tercer hijo bueno

pero obviamente no va a salir la iniciativa creo que la enmienda del partido nacionalista vasco y el partido socialista

hecho anuncios a bombo y platillo que han ocupado páginas de periódicos teleberris y luego obviamente juzgará la ciudadanía vasca se quedan en lo que se quedan y lo que se corrobora nuevamente

las familias vascas desde luego no están en el lugar que deberían de estar para cualquier gobierno que se precie y que tiene un problema con una de las tasas de natalidad más bajas no solo del resto de españa

señora garrido yo le he dicho antes que le iba a contar una historia y no voy a faltar a mi palabra

que solicitó la ayuda para cuidado de personas dependientes en noviembre estamos en febrero y todavía no tiene respuesta

técnicamente las personas que se acojan a estas ayudas económicas

seis meses para poder responder desde el gobierno seis meses seis meses mientras las personas se reducen el salario y esperan habrá quien pueda

esto no aparece en ningún sitio en su enmienda

el monto económico y a nosotras pues nos preocupa que solo se puedan acoger a estas ayudas

más necesidades nos preocupa también que haya un monto de ayudas económicas de veintisiete millónes a trabajadoras para el cuidado de hijos e hijas de uno coma cinco millónes

todas calificadas por el informe de evaluación del impacto de género de la memoria presupuestaria como ayudas perversas

y que la única que no está calificada como tal que es la de contratación para personas cuidadoras tenga un monto

nos parece curioso voy a decir que también vamos a poner en valor la famosa medida estrella pero esperaremos a verla

que tendrá trampas como usted anunciaba de todos modos no voy a seguir entrando en esta relación de amor odio que tiene usted con el gobierno y me voy a centrar en el señor urrutia me voy a centrar en el señor urrutia

parecen las tablas de moisés me sorprende eso sí que por primera vez sea más larga que la mía yo en cualquier caso voy a tratar de explicarle por qué no vemos su enmienda el primer punto que ustedes tienen se anunció por primera vez en marzo de dos mil dieciocho desde entonces lo han anunciado al menos

y la semana pasada señor erkoreka volvió a sacar pecho de la misma medida nada nuevo punto dos extraído literal del decreto ciento veintiuno barra dos mil ocho de treinta de julio de modificación del decreto de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo nada nuevo y ya aprobado

en noviembre de dos mil dieciocho tampoco nada nuevo punto número cuatro extraído de los acuerdos alcanzados en este parlamento y no a propuesta del pnv durante el monográfico de familia de marzo de dos mil dieciocho yo como decía la señora kortajarena creo que estos puntos

si no con este parlamento por lo menos con la ciudadanía y que tienen que cumplir entonces entienda

que hablen de mí en la intimidad pero yo siempre soy una mujer abierta al diálogo y al consenso es verdad que desde el venir de otro lugar tal vez tengamos que trabajar y hacer una reflexión por generar un lenguaje común

que no entonces en cualquiera de los casos le agradecí su propuesta de transacción y es verdad que no insistí porque no soy de las que andan

me gusta ser clara y le dije claramente que usted había eliminado de nuestra enmienda toda la mamía y se lo digo en una palabra que entendamos los dos porque así seguro que

permítame que en esto de que podríamos llegar a un acuerdo en el futuro si no queda escrito yo no me fíe porque ustedes no paran de hacer anuncios

no cumple por qué me voy a creer que va a salir adelante el de los cuidados si no han salido adelante acuerdos que hemos alcanzada en esta cámara con los servicios sociales con la rgi con

por qué usted me acusa de tener pocas ganas de llegar a un acuerdo yo creo que hay una base que tenemos que trabajar porque no compartimos y cuando uno construye sobre pies de barro corre el riesgo de que los cimientos se hundan besterik ez

gracias presidenta mire señora garrido

donde gobiernan hubieran puesto en marcha medidas como las que están puestas en marcha en esta comunidad

ojalá porque hubiera sido mucho mejor para esas comunidades autónomas yo creo que aquí contamos con una buena estrategia y una estrategia global

del tiempo y estoy de acuerdo con la señora guanche cuando ha hecho

responsabilidad también en las dificultades que padecen las familias con los recortes y la reforma laboral que ustedes pusieron en marcha

de hoy me ha dado la risa porque he leído

del señor casado que dice que para pagar las pensiones hay que pensar en tener más hijos y menos en abortar y me ha entrado

como se han bajado en la reforma laboral para haber conseguido mayores bases de cotización etcétera etcétera y probablemente así también si no se hubieran bajado esos salarios y si no se hubiera aplicado esa reforma laboral

que tienen después de aplicar todos esos recortes y ustedes tienen responsabilidad en ello luego vienen aquí

por parte de esta comunidad autónoma y con eso se quedan complemente tranquilos y parece que ustedes hacen o quieren hacer

maravillosas y ya hemos dicho que esas políticas por cortoplacistas pueden ser un complemento pero no pueden ser las únicas medidas sino que tienen que estar metidos en una estrategia

los objetivos que se pretenden conseguir y señora guanche

ya lo ha dicho también la señora kortajarena usted ha hecho referencia a un sistema vasco de cuidados

debatir etcétera etcétera pero contamos con un sistema vasco de servicios sociales donde también entran los cuidados y donde también hemos debatido

tiene que seguirse desarrollando y que ese desarrollo ha ido más lento

de lo esperado en un principio y es ahí donde tenemos que centrar ahora mismo yo creo

nuestros esfuerzos aunque se pudiera pensar o estudiar

que queremos que siga aplicándose y sin más

socialista porque creemos que es la mejor propuesta

ekimena señora garrido usted

muchas cosas en sus dos turnos de intervención a mí por momentos me resulta frustrante mire yo a los compañeros que

cuando usted comienza a hablar le digo lo que va a decir y en el orden

el lehendakari anunció no sé cuántos millónes en una precampaña la consejera anunció no sé qué en el pleno monográfico

es decir el discurso que hace usted sobre todo en su primera intervención

si analizásemos en los sucesivos debates que hemos tenido sobre esta materia es que

y siempre dice lo mismo aunque resulte por momentos extemporáneo yo

pida por ejemplo usted esta información sobre el programa treinta y uno mil doscientos cuarenta de política familiar y comunitaria y si no mire

lo pongo a su disposición y hay podrá contrastar las ayudas en torno a la administración

ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar y las ayudas de política familiar hijos hijas y conciliación pone usted el ejemplo de francia y es cierto pero resulta es que la consejera no le ha dicho

que francia comenzó esto a partir de la segunda guerra mundial y

es una certeza como es una certeza el hecho de que en este momento en este momento

no llega a los objetivos y eso es un hecho y eso en fin

por qué ser un demerito para la señora consejera luego habla usted mucho de que ciertos recortes comenzaron en tiempo

también con su voto por lo tanto oiga lecciones lecciones las justas habla usted de nada ambición yo lo que no veo es ambición en su discurso lo que le he dicho a la señora kortajarena lo que observo es que la que no ha cambiado de paradigma

es usted y en cuanto a la señora guanche mire nosotros cumpliremos y haremos por cumplir nuestros compromisos

porque el hecho de que la iniciativa original fuera tan parcial

sesgada en mi opinión hace que muchas veces en el plazo de enmiendas hagamos enmiendas en el que empezamos a meter más cosas que desde luego caben en esta materia que es muy amplia muy transversal

lo que acabamos haciendo todos incluido yo y mis propuestas de transacción incluso mi enmienda

parece más que una proposición no de ley parece lo que le decía las tablas de moisés con lo cual acabamos descentrando el tema de lo realmente importante

no consideramos que hacemos todo bien no no consideramos que hacemos todo bien

ustedes consideran que todo lo hacemos mal en cuanto al sistema de cuidados

no tenemos porqué llegar a un específico sistema de cuidados no tenemos porqué pero lo que sí tenemos que hacer es visibilizar esa labor

absolutamente femenina y lo que tenemos que hacer es cuidar a las personas cuidadoras y tenemos que empezar la estrategia por ahí por ahí en nuestra opinión y luego esta estrategia podría llevarnos por qué no

a un sistema vasco de cuidados del que usted hablaba usted hablaba de que

actuamos con pies de barro bueno no sé si establecemos

eskerrik asko señora garrido yo creo que usted misma ha demostrado que el tema este de que más dinero más dinero más dinero pues no sirve para nada los datos lo evidencian y también me gustaría recordarle que muchos de esos recortes que se han sustanciado en materia de políticas de familia se han sustanciado con su apoyo en los presupuestos de todas formas

el resultado que dan en las políticas de natalidad ese

veremos qué resultado da eso en políticas de natalidad a la señora sánchez le diría que la verdad

se dicen las cosas porque la señora artolazabal dijo algo bastante parecido salvando las distancias de los pocos filtros que tiene el señor casado pero también la señora artolazabal dijo que teníamos que fomentar la natalidad para pagar las pensiones y yo creo que evidentemente

no creo que tengamos que tener más hijos para mantener un sistema quiero decir nuestros cuerpos

no se utilizan para fines políticos son otras cosas yo creo

con respecto a los efectos que puede tener la reforma laboral en materia y le animo que ahora que están ustedes en el gobierno deroguen esas reformas y podamos estar hablando de otras condiciones

aipatzen zenuen baita ere el tema de cuidar a las cuidadoras cuidadoras hay muchas personas que son cuidadoras

que trabajan en la atención domiciliaria todas esas mujeres que trabajan en precario profesiones totalmente feminizadas y precarias que están en huelga

en muchos sitios y a las que el desarrollo normativo por ejemplo de la ley de servicios sociales les ofrecería otro marco

esas medidas de cuidar a las cuidadoras pero el concepto de cuidadora también hay que ampliarlo y que hay que tener en cuenta eta gogoratuko duzu itunaren

hori da planteatzen duguna de todas formas tanto amor y odio